señorías buenos días a todos y a todas consejero bien con brevedad puesto que hay un acuerdo en relación con la moción que
se ha presentado a raíz de la interpelación que el otro día se sustanciaba en la cámara en relación con mesedez mesedez mesedez

de cultura en relación con patrimonio documental judicial pues bueno hemos presentado esta moción y hemos llegado a un acuerdo general en relación con las cuestiones el otro día ya se decía lo decía yo desde la tribuna que

de la gestión del patrimonio documental judicial del patrimonio en definitiva histórico o documental de la comunidad autónoma del país vasco después de haber hecho análisis de documentación o trabajo de lo que habían sido las actas de las juntas de expurgo judicial

los criterios de destrucción de documentos criterios

a juzgados de instrucción a juzgados de euskadi esa junta se reunía desde dos mil seis pero bueno había una cosa que identificábamos como de mejora en el estudio de la documentación

parlamentarias sustanciadas la legislatura pasada pues bueno se había detectado la necesidad

lo que se había identificado como diseñar elaborar aprobar criterios normativos que o criterios o directrices

de documentación judicial bueno había habido un análisis había habido un análisis de documentación había habido una consulta también

que se identificaba la necesidad de nuevos criterios y directrices y desde luego

por el funcionamiento de la junta de expurgo la composición

de manifiesto en la sustanciación de la interpelación bien

participa el gobierno vasco con sus informes en teoría con su presencia con su capacidad de decisión es decir el gobierno vasco tiene la competencia en patrimonio documental y en ese sentido tiene mucho que decir y todavía tiene

la aplicación de esos criterios y de esas directrices con las que la junta de expurgo debe funcionar identificábamos también en las actas que en alguna de las reuniones

representante del gobierno vasco no ha asistido en alguna de las actas de las once reuniones que esa junta de expurgo

hay que arreglar y seguramente tienen que ver con la metodología tienen que con la composición

en teoría con el trabajo vamos a decir que es competencia del gobierno vasco

la conservación del patrimonio documental del archivo histórico documental y

en un ámbito donde lo que se toman es decisiones de destrucción de patrimonio documental o de documentos en teoría que hay que desde luego pues trabajar de otra manera y entendemos que esas son las claves

la destrucción y conservación de la documentación judicial se regula sí en todo el estado por el real decreto

modernización de archivos judiciales por esta norma se creó la figura de las juntas de expurgo de documentación judicial una por cada comunidad autónoma dependientes

son las encargadas de identificar todos los expedientes judiciales civiles penales contenciosos

que la administración competente en materia de patrimonio histórico eleve un informe con carácter vinculante sobre aquellos expedientes o documentos judiciales que por su valor histórico documental deberán ser preservados ahí está aquí está la actuación la que debe ser la actuación del gobierno vasco por ello el artículo

un técnico superior especialista en archivos designado por la administración competente en materia de patrimonio histórico es decir que finalmente sí que corresponde al departamento de cultura del gobierno vasco en este caso

a la administración de justicia aquellos expedientes que deben preservarse por su valor histórico cultural bien

de conservación del patrimonio histórico cultural el patrimonio documental no

a la administración judicial que no gestiona archivos históricos ni tampoco a la administración general del estado tampoco tiene por qué dar normas comunes

del patrimonio judicial del patrimonio documental judicial al que nos hemos referido bien yo me refería el otro día a una serie de sumarios que podían haber sido destruidos en relación con lo que han sido las actas de las juntas de expurgo bueno hacía una referencia el otro día que no voy a repetir de nuevo algunos dicen que esos documentos están pero fruto del análisis de las juntas de expurgo esos documentos no están es posible que

en este momento el análisis de las juntas de las actas de las juntas de expurgo calificarían una serie de documentos muy importantes como de destruidos bueno si están por algún otro lado pues bienvenidos sea pero el asunto es que identifica una necesidad clamorosa de directrices o de criterios específicos en relación con el funcionamiento de las juntas de expurgo

el propio consejero de cultura el otro día decía que desde la formación de este ejecutivo ha sido un asunto que ha atraído el interés y la preocupación tanto de nuestro

que los dos departamentos estamos trabajando conjuntamente efectivamente este es el impulso definitivo para que esas directrices y esa normativa

realizar algunos cambios en la actuación y composición de esta junta es decir uno de los elementos fundamentales han trascurrido más de doce años desde la creación de la misma y vista la evolución

de gestión de la documentación judicial y por ello decía también el señor zupiria que son necesarios cambios tanto en relación a la metodología como en relación a la propia composición de la junta y fruto de la detección de esa necesidad el gobierno vasco está trabajando en esa cuestión bueno ese es el elemento fundamental y por eso se ha presentado una

parlamentarios a los que agradezco su aportación constructiva yo creo que se ha avanzado en lo que es

y justicia a que elaboren esa propuesta y la remitan a la junta de expurgo para actualizar los criterios de procedimientos de eliminación de la documentación judicial

dicho proceso intervendrán voces externas autorizadas en el campo de la archivística en la gestión me doy cuenta que hay un error

documental y la conservación del patrimonio documental judicial es decir bueno eso es un error que pido a los servicios de la cámara puedan corregir es gestión documental

y también como segundo punto se considera necesario que dichos criterios y procedimientos se basen en una valoración de los documentos que se materialicen en el establecimiento del calendario de conservación de las series documentales

metodología con la cuestión de trabajar por parte del gobierno vasco

documental y de selección de documentos se considera prioritaria la conservación de aquellas relacionadas con los derechos humanos y la memoria histórica algo que venía como aportación por parte de otro grupo parlamentario y asimismo el gobierno vasco en colaboración con la junta de expurgo estudiará las medidas más oportunas para adecuada preservación buen estado de los expedientes no expurgados y los resúmenes

se necesita mejorar también en esta faceta y algún grupo parlamentario lo ha identificado y lo ha traído como elemento de referencia y desde luego no podía no ser tenido en cuenta y

se recomienda a la junta de expurgo la suspensión de procesos de eliminación de la documentación hasta que no se produzca dicha actualización de criterios y procedimientos en fin esta es

a la moción presentada por nuestro grupo entendemos que es una cuestión evidentemente interesante en lo técnico pero también en lo que es la

andrea egun on consejero egun on guztioi parlamentario carmelo barrio demócrata cristiano del pp presenta una moción consecuencia de interpelación relativa a criterios de expurgo del archivo de euskadi en relación

sin duda tiene su interés y le agradecemos que haya insistido en la moción tiene su interés porque el señor barrio no se refiere a los procedimientos de gestión administrativa de expurgo de documentos judiciales que se desarrollan jurídicamente en euskadi

referida al patrimonio cultural vasco y su gestión o más en concreto al decreto doscientos treinta y dos barra dos mil de veintiuno de noviembre referido al reglamento de servicios de archivos y normas reguladoras del patrimonio documental del país vasco

de veintidós de julio que se refiere efectivamente a la organización y funcionamiento del sistema de archivo de la administración pública de euskadi o en el ámbito del estado español

de modernización de los archivos judiciales o la ley orgánica quince barra noventa y nueve del trece de diciembre

con la protección de datos de carácter personal el señor barrio

técnico administrativo plantea criterios y directrices para que las decisiones que adopte la junta de expurgo judicial de la comunidad autónoma vasca sean

científica o política o sociológica para lo que se propone recurrir a expertos bueno pues estamos de acuerdo en elkarrekin podemos

procedimientos de carácter técnico sino de criterios en clave de las ideas criterios ideológicos criterios criterios culturales que tienen que ver con la cultura que se percibe en nuestra democracia y efectivamente no podemos estar más de acuerdo qué hacen las juntas de expurgo

o la transferencia de los mismos a la administración competente en materia patrimonio histórico además se publican actas como bien ha comentado el parlamentario carmelo

sin embargo siempre hay que tener en cuenta el artículo cincuenta y cinco punto dos

prohíbe destruir documentos con valor probatorio de derechos y obligaciones de personas y entes públicos

estos son los archivos estos son los procesos judiciales por eso son importantes los criterios de expurgos de documentos de los procesos judiciales porque al menos

conocer bien nuestra memoria histórica y esto haya que hacerlo bien en clave de criterios democráticos y de criterios de respeto a los derechos humanos

de algunos criterios queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y nuestras hijas conozcan la verdad de nuestra historia

ochocientos personas entre los años cincuenta y nueve y dos mil once que extorsionó secuestró aterrorizó a miles de personas de este país pero antes

con sus procesos judiciales abiertos o cerrados fueron asesinadas encarceladas torturadas extraditadas y desterradas

miles de familias de nacionalistas quedaron rotas

miles de socialistas anarquistas comunistas republicanos y sindicalistas fueron encarcelados fusilados torturados desterrados

sus expedientes judiciales existen se intentó por los métodos coactivos más violentos anular la conciencia nacional de pertenencia a una comunidad la comunidad vasca su lengua su cultura y sus símbolos más de cinco mil ciudadanos y ciudadanas de este país

antes durante y después de la existencia de eta quiero que estos documentos como bien propone el señor barrio no se destruyan

que se estudien que se conozcan y que se investiguen y hasta escasamente diez años recuerdo la ley cincuenta y dos barra dos mil siete de veintiséis de diciembre de memoria histórica

no se disolvieron unos cuerpos de represión no se depuraron de fascistas los policías políticos sociales que nos detuvieron

los cuadros del estado mayor del ejército preñado en su cúpula de personajes autoritarios incultos y fascistas que soñaban con golpes de estado en la sala de banderas como bien sabían

aquellos barros trajeron estos lodos quiero como el señor barrio que nuestros hijos que nuestras hijas que los hijos de sus hijos conozcan la memoria histórica de nuestro pueblo que no se destruyan los expedientes policiales que lo explican que escuchen a las víctimas a los asesinos que han considerado que estuvo mal lo que hicieron

no para no dormir sino para no olvidar lo sucedido porque sucedió así elkarrekin podemos apoyamos que se establezcan criterios y directrices

se solicite la opinión de expertos como bien plantea el parlamentario carmelo barrio a historiadores y también asociaciones acreditadas de derechos humanos

con la ley de memoria histórica mis compañeros de parlamento

edurne lander iñigo julen tini nacieron después de la dictadura

necesariamente la gente tiene que saber las cosas que han pasado cómo han pasado quiénes son responsables

ailegatzen egon nazenean parlamentu honetara y la verdad es que me sorprende

no me sorprende pero sí que lo tengo que poner de manifiesto

en su enmienda transaccional porque mejora la suya y porque además conoce usted que lo que planteamos ha sido acordado con la judicatura en concreto con el presidente de la junta de expurgo y con el presidente del tribunal superior del país vasco quien nos ha dicho que además lo hagamos así porque ese es su interés que sea así usted lo recoge

en la enmienda transaccional y de repente me dice usted que no puede firmar con nosotros

estaría dispuesto a hacerlo sino porque hay alguien por encima

que vigila todo que le prohíbe a usted firmar o acordar con euskal herria bildu pero no le prohíbe coger lo que euskal herria bildu hace introducirlo en la enmienda y entonces yo le voy a decir yo no tenía intención de hacer una polémica de este punto porque me parece que cuando hay cosas que como décimos en bilbao y en bizkaia tienen fundamento pues hay que hacerlas y esto

que tiene fundamento pero claro el problema es que usted introduce lo nuestro como si fuera suyo como si fuera de los demás grupos

me dice que lo apoyemos y lo vamos a apoyar en su momento lo apoyaremos ya veremos después en la votación si tenemos que solicitar algo en concreto o no ya lo veremos pero hombre yo como usted insta mucho a la gente le encanta instar al gobierno vasco a no sé quién y a no sé cuál pues yo le insto a que madure

nosotros y nosotras que somos tan críticos con el partido popular

lo que pasa en el partido popular que hablamos de corrupción que vemos las cosas cómo están

porque cuando una cosa tiene la trascendencia que tiene esta para lo que sirve no hubiéramos tenido ningún problema en firmar con ustedes a pesar de todo lo que pensamos de ustedes pero ustedes siguen manteniéndose en el pasado siguen manteniéndose en esta situación y yo por esto le insto a que madure y también le insto a otra cosa mire usted

haga propuestas con fundamento en cuestiones que tienen que ver con los derechos

con política penitenciaria con justicia social con otro tipo de cuestiones madure en eso

y haga esas propuestas porque igual resulta que haciendo esos cambios podemos llegar a más acuerdos y podemos cambiar las cosas a mejor y también haga otra cosa recapacite y piénsese

presidenta miembros de la mesa consejero señorías buenos días a todos y a todas pues volviendo al presente es verdad al debate presente y volviendo al debate que nos ocupa yo

recomiendo que cuando se trata de lograr los consensos el esfuerzo tiene que ser de todos y de todas y para eso tenemos que volver al debate que nos ocupa en cada momento y al tiempo que tenemos en el presente y ahí me quedaré porque no voy a participar de mayor polémica

la contestación del consejero de cultura las intervenciones que ha habido y me han precedido no voy a extenderme de cuál es el objeto de debate cuál es la función de la junta de expurgo y qué es lo que podemos lograr o ayudar a esa junta en el objetivo de

al patrimonio documental de nuestro país nosotros tenemos claro que es necesaria esa conservación del patrimonio documental judicial que tienen que estar

del país tanto el de euskadi como los territoriales en su caso porque contribuyen a hacer nuestra historia y a guardar nuestra memoria

agradecemos mejor dicho la labor que se realiza en esas juntas y esperemos que la transacción realizada les favorezca en la misma incluso en la de mantener

un nuevo protocolo que concite los consensos adecuados con ese objetivo hacer historia y conservar nuestra memoria señorías estamos hablando de la memoria histórica de nuestros tribunales algunas personas que estamos aquí y que hemos

estampado en el lomo estanterías repletas de archivadores llenos de expedientes judiciales que han

al tiempo se trata de legajos de pequeños y grandes pleitos divorcios desahucios desastres naturales despidos accidentes laborales expropiaciones pequeños y grandes delitos abominaciones también de nuestra historia

acontecimientos históricos hitos políticos todos ahora con un dedo de polvo y ese color sepia que delata su antigüedad

la judicial la que sale a la luz si se escarba en los archivos judiciales de cualquier lugar de españa

a buen término pero son papeles muchos de ellos que son

lo único que añadiré que es de la memoria histórica lejana y de la más reciente también

que una enumeración si no es exhaustiva agravie a los que no se citen en este caso y no quiera agraviar en este debate a nadie porque la unanimidad

historia y la memoria con la conservación de los documentos judiciales en el país vasco me parece que no lo merece de esa otra memoria histórica

es inversamente proporcional al espacio que ocupan y conservar preservar esa otra por su valor histórico documental

de nuestro patrimonio y esa es la función más relevante y esa es la función que mediante esta enmienda transaccional solicitamos que se realice en primer lugar efectivamente yo creo que desde los grupos hemos contribuido a mejorar la inicial

porque ellos son otro poder y creo que eso en esta enmienda transaccional está recogido igual que al poder legislativo y al ejecutivo el poder judicial no le tiene que instar ni obligar a conservar de una determinada manera o a actuar en favor de la consecución del objetivo de una

en común que solicitaban algunos de los jueces para ayudarles en esa labor de conservación vamos a ver cómo

obligue al legislativo y al ejecutivo a decir cómo lo tiene que hacer encontrando siempre las mejores fórmulas no voy a repetir la transacción porque ha sido leída rápida

que para las socialistas vascas esta no es una cuestión baladí ni de segundo nivel como decía el señor uria

hacen historia y guardan la memoria la memoria del pasado es en nuestro caso tan peculiar como testimonian todos esos casos particulares

en la vida de la ciudadanía y de los pueblos la memoria colectiva

la conciencia de determinados valores y la capacidad de proyectarlos hacia el futuro y está presente sobre el tapete político esa memoria y creemos que la contribución que hacemos hoy conservando los documentos judiciales que formarán parte de ese patrimonio

ayudarán a lo mismo porque en algún momento tendremos la necesidad del olvido incluso los que más hayan sufrido

pero no queremos que haya amnesia por parte de los poderes públicos yo creo que hoy todas todos nos comprometemos con esa obligación cultural histórica judicial

y con eso quiero acabar la memoria colectiva

futura hay muchos ejemplos para hacer política de memoria pero si queremos tener la nuestra

y el más reciente una de ellas va a ser actuar para ayudar a la junta de expurgo a conservar determinados documentos judiciales que tengan aún auténtico valor cultural histórico de investigación político o social

algún día en el futuro de verdad se acabe debatiendo y votando alguna propuesta haciendo alguna normativa en este sentido en el que ya no hagamos la polémica y esta memoria

mediante la conservación de lo que son documentos objetivos judiciales no sea objeto de conflicto sino de acuerdo muchas gracias eskerrik asko romero

ni en la política penitenciaria yo voy a hablar en concreto del tribunal de expurgo y al asunto archivístico

que la moción que debatimos en este primer punto del día es de sentido común

a dicha moción en esta moción de origen se solicitan dos cosas y es que se establezcan las directrices por las cuales se rige

y que la labor de expurgo se paralice lo recomendamos no instamos hasta que se implanten dichas directrices yo me atrevo a decir que todos los grupos estamos de acuerdo con estas aseveraciones

bastante amplio con las aportaciones del resto de los grupos

señor imanol agote que es director de patrimonio del departamento de cultura y política lingüística y lo cierto es que el trabajo que de fondo se hace desde el gobierno en el ámbito de la conservación patrimonial y judicial es intenso así como las líneas de trabajo en lo concerniente a la conservación de la misma la tarea

y lo quiero explicar de una forma gráfica para que se entienda cuál es hacia dónde van enfocados los esfuerzos del gobierno imaginemos que tenemos un arcón congelador en el cual tenemos

de alimentos la información la forma en la que están agrupadas y etiquetadas actualmente es

lo que queremos hacer es los parámetros que queremos incluir es la caducidad y el tipo de alimento es decir que ese etiquetado esa forma en la que se agrupan sea más descriptiva y de esta forma en el expurgo sepamos qué interesa y qué no interesa trasladando esta metáfora al

como he dicho tenemos unos expedientes correspondientes a un juzgado en concreto a un año en concreto y agrupadas por ramas del derecho creo que en total hay diecinueve

para ser conservado debe haber una evaluación documental

más detallada que derive en un calendario de conservación donde los documentos se agrupen por funciones y no por estructura

actualidad dado que a la hora de eliminar expedientes hay delitos y crímenes que nos interesan de una forma especial los que mencionaba el señor barrio en su interpelación al consejero varios asesinatos de eta y de la triple a los ponía como ejemplo

no hay otra forma de hacer un expurgo eficaz

en hacer más descriptivo y práctico ese etiquetado y es ahí donde está

me consta que camina la administración vasca este es un cambio

trabajo que debe enriquecerse el conocimiento y la aportación de distintos ámbitos

como son la conservación de patrimonio y la justicia dado que la gestión

barreras informáticas e integrar procesos administrativos con una visión de conjunto con una visión de proceso

sí gracias presidenta con su permiso desde el escaño y no sé si

yo creo que he madurado fíjese usted cómo he madurado que le aguanto el chorreo a la señora goirizelaia y ni me inmuto

mientras vote a favor de la iniciativa donde todos hemos participado

avanzar y en ese sentido yo creo que hay un poco

unas necesidades que la administración parece ser

identifico el problema lo pongo de manifiesto trayendo una interpelación una moción consigo un acuerdo que parece ser que va a ser unánime en relación con unas necesidades de establecer criterios y directrices donde escasean esos criterios y directrices yo creo que es un síntoma de madurez desde luego y sobre todo vuelvo a decir que las broncas de la señora goirizelaia

de entender que uno cuando trabaja recoge los argumentos de los demás y sus posiciones y además ya sabe usted que el proponente en estos casos es

su iniciativa y que puede entender que puede recoger las aportaciones de otros grupos parlamentarios plasmarlas y luego gestionar la iniciativa efectivamente yo creo que va a ser una iniciativa que va a ser votada a favor por todos los grupos parlamentarios salvo que usted ahora

se practica una identificación del problema y la cámara adopta un acuerdo parlamentario para instar al gobierno a que haga una serie de cuestiones yo creo que ese es el elemento fundamental

esa cuestión o ese procedimiento parlamentario o esa pose o esa forma de negociar parlamentaria para

enfadarse conmigo y para decirme una serie de cuestiones bueno pues vote a favor vote a favor

ha aportado y ese es el elemento fundamental y desde luego habla de madurez pues no sé

pidiéndonos que participemos en la ponencia de paz y convivencia pues

para que participásemos en la ponencia de paz y convivencia ustedes tienen la llave precisamente por esa falta de madurez que les caracteriza al no
condenar las acciones de eta muchas gracias eskerrik asko

sí solamente un pequeño comentario esta interpelación que es una interpelación sencilla

el consenso de los cinco grupos políticos de la sala no intentaría caer en lo que llamamos cultura administrativista de las instituciones normalmente

municipios departamentos la propia junta de expurgo tienen tendencia tenemos tendencia a organizar la cultura de la gestión de los derechos de forma administrativa

no sea el único camino hemos intentado aportar y así lo queremos resaltar que la gestión de la cultura de los derechos sociales también tiene que ver con criterios

está bien tener culturas administrativas para organizar de forma objetiva los derechos y la accesibilidad a los derechos pero está también tener criterios de derechos para administrar los mismos esta ley sencilla

lo que intenta es impulsar que la junta vasca en este caso expurgo de documentos judiciales tenga criterios de culturas de derechos para expurgar documentos no solamente criterios técnicos y administrativos solamente eso

si usted ha madurado lo suficiente le queda todavía un ratillo pero le voy a felicitar porque bueno lo que usted dice es que está haciéndolo pues nada más siga así

haciendo propuestas como le decía que nos permitan avanzar en clave de derechos y libertades eskerrik asko

la responsabilidad social corporativa no es suficiente porque no es vinculante

lo acordado en los tratados comerciales es decir derecho duro ejecutivo y vinculante para los negocios derecho blando de cumplimiento voluntario para los derechos humanos

éticos sus buenas prácticas aparentemente no existen violaciones de derechos humanos todo parece

algo que contrasta mucho con la visión que llega de la otra parte así que a quién debemos

nuestra propuesta busca que analicemos las dos perspectivas que contrastemos las dos versiones y que no ocultemos el reverso de la internacionalización y sobre todo

para que las personas afectadas puedan tener posibilidades de defenderse eso es lo que se pide ni más ni menos y es algo

cataluña está trabajando en ello francia ha aprobado una ley para el control de las empresas internacionalizadas en holanda

en el extranjero naciones unidas trabaja en un tratado internacional vinculante para el control de las empresas trasnacionales y aquí

para ilustrar lo que estoy diciendo permítanme leerles una parte de la valoración que hace friends of the earth

y dice desde hace tiempo se ve que los enfoques voluntarios de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de las empresas no son efectivos francia ha adoptado una ley vinculante que barca todas las violaciones de derechos humanos y genera obligaciones vinculantes para las empresas matrices y subsidiarias a lo largo de toda la cadena de suministro

en planes de vigilancia públicos anuales entre los impactos se incluyen los vinculados a sus propias actividades a las de las empresas bajo su control

y pongo un ejemplo se acuerdan de rana plaza en bangladesh más de mil cien personas murieron por un derrumbe de una fábrica ruinosa en la que trabajaban subcontratas

les pasó algo no salieron de rositas y con este tipo de mecanismos

aunque tenga sus carencias de la responsabilidad en toda la cadena de suministro incluidas las subcontratas por eso

para rebajar el contenido de la ley y para que el tratado de la onu no prospere porque saben lo que están haciendo así que les dejos dos preguntas qué les sugiere esto y por qué ustedes no están dispuestos a nada aquí

y tampoco va a dejar de existir porque la diplomacia vasca oculte todo esto en el plan de internacionalización de la industria vasca zeren lastima bat da

a bombo y platillo erakutsi duzue

behera así que se ha anunciado el viaje con un sugerente título

viaja en la delegación arantxa tapia viaja la secretaria general de acción exterior

y encabeza la delegación el propio lehendakari esto da una buena muestra

de la empresa vasca eso sí hay quien no viaja no viajan sindicalistas vascos ni en la agenda se atiende a la situación de los sindicatos colombianos las ong vascas que trabajan en colombia no han sido invitadas

solo empresas buscando beneficios en el exterior

el mundo como campo abierto para los negocios y las consecuencias sobre el terreno pues si eso ya total después no y la agenda llama la atención también

incluye un encuentro con responsables de instituciones y entidades colombianas dedicadas a la innovación el transporte la energía el desarrollo empresarial incluye reuniones bilaterales con diversos ministros

incluye reuniones con representantes de empresas vascas instaladas en colombia pero nos quedan dudas se va a abordar la situación de conculcación sistemática de derechos humanos en colombia

líderes comunitarios y sindicales que aún se siguen produciendo

no creen ustedes que es importante que las delegaciones oficiales incluyan a agentes diversos y que las agendas previstas incluyan análisis de derechos humanos

únicamente como una oportunidad para la captura de mercados por parte de las empresas vascas nik besterik gabe

eskerrik asko egun on bueno debatimos en conjunto una moción de

de nuestro grupo parlamentario y una transacción que hemos acordado entre ambos grupos por una parte mostramos nuestra preocupación por las prácticas que ya

iberdrola y también hablamos también de un tema que ya hemos hablado en comisión tabú y que es el papel de las

en el exterior lo presentamos en un momento preocupante y en el que la ciudadanía está preocupada

y digo abusos de poder porque estas empresas que estamos hablando de iberdrola son desgraciadamente el verdadero poder estamos en un momento además en el que estas empresas

por desposesión lo hacen mercantilizando nuestros servicios públicos en los que ganan evidentemente ellos ganan también con el sistema de fijación de precios

político para seguir ganando y además no contentos también con ello siguen

públicas pagando las facturas de nuestros ciudadanos y ciudadanas que no pueden hacerle

aurrean oso erraza da sencillo y justo un mensaje claro de la máxima institución de euskadi que muestre su preocupación por los abusos de esta

vasca pero vamos más allá y me imagino algunas de las reacciones que va a ver eusko jaurlaritzari eskatzen diogu

egokia y lo pedimos pedimos un informe cuantitativo para saber lo que hemos pagado de más a estas empresas porque son empresas en este caso iberdrola sancionada y multada investigada en este momento pero pensamos que desde el gobierno vasco tenemos que dar un paso más e intentar recuperar para las arcas públicas lo que se ha pagado

y no creo que esté haciendo demagogia que no sería tan malo que el gobierno vasco ejerciendo su soberanía como institución pública dialogase con esa empresa que supuestamente tiene

no tiene que ser monetariamente podría ser con una moratoria a la hora de hacer frente a las facturas que pagan o que no pueden hacer frente nuestros ciudadanos y ciudadanas vascas y que no tuviéramos que hacer frente a esas facturas desde las instituciones públicas

para controlar esos pagos pues actuemos también con quien abusa

y de las ciudadanas y la segunda parte de esta transacción que hemos presentado en el día de hoy y dentro

y que es una preocupación por el cumplimiento de los derechos humanos laborales y medioambientales en el ejercicio que hacen nuestras empresas vascas o de las empresas que tienen sede en euskadi mejor dicho en el exterior porque es verdad y sé que me lo van a decir que hablamos de pymes

analizarlo hablamos sobre todo de corporaciones como es el caso

tiempo y esta vez se trae el debate con el ejemplo de iberdrola

de una licencia casi poética porque de ejemplo de iberdrola podríamos hablar en bolivia

compró la empresa energética de bolivia por cierto felizmente recuperada por el gobierno de evo morales pregunten si no por el ejemplo de iberdrola también a los indígenas brasileños desplazados por las actividades y por la expulsión de tierras de grandes hidroeléctricas entre ellas alguna con participación

incluso por la justicia mejicana pregunten por ese ejemplo

el compañero mikel otero es que dentro de esos grandes valores de la estrategia basque country dos mil veinte también esté presente

titulares porque es verdad que hoy hay un viaje esta semana hay un viaje a colombia y se me ocurre que además de hacer negocios podíamos preocuparnos de lo que está pasando en colombia de los problemas que hay con el proceso de la conculcación sistemática de los derechos humanos que hay en ese país porque

los asesinatos de líderes sindicales sí de líderes sindicales y de líderes comunitarios creo que no y si no se pone y se trae en documento en el que se establezca así lo reconoceremos o

las empresas extranjeras algunas europeas algunas estatales que operan en el país y que son sostenedoras de lo que está

de negocio creo que no podemos mirar hacia otro lado cuando pasan cosas de este tipo y creo además que este parlamento aprobó una proposición no de ley que instaba al gobierno a hacer ese tipo de medidas porque además pensamos que lo que estamos pidiendo es mejorar la imagen exterior

exterior en defensa además del comercio y del turismo vasco en defensa de los derechos

en naciones unidas se está trabajando en ese sentido hay un grupo de trabajo que está trabajando en un tratado internacional para controlar en el marco del derecho internacional

vanguardia de ese sentido pero creo que algunos están más tranquilos o más cómodos en dejar tranquilos a los colegas con sus negocios porque lo comentaba también el compañero mikel otero en francia

ley pero una ley al fin y al cabo que supone un gran avance para que las empresas trasnacionales y las empresas francesas con actividades en el exterior tengan que rendir cuentas a sus actividades ante los poderes públicos

todavía vivimos en otro mundo o más cerca en cataluña

trabajo se ha aprobado la creación de un centro de estudio y de evaluación

de los papeles o del papel de las empresas catalanas en el exterior un centro que además va a disponer de instrumentos para velar por el cumplimiento de la legislación vigente en los derechos humanos y además un instrumento que como dice la transacción que hemos presentado va a tener la participación

catalana pensamos y además hay un documento del gobierno vasco que va en ese sentido que para ser coherentes en políticas

bajo fórmulas o bajo otras fórmulas de comercio y de inversión fórmulas que en la línea de la ley francesa y del centro que se ha aprobado en cataluña vayan al control democrático de las inversiones y del control democrático sobre los beneficios

las exportaciones y puedan controlar lo que hacen nuestras empresas las exportaciones las importaciones o las inversiones

pública y hay una estrategia pública de internacionalización pero que se tiene que asumir con valores de derechos humanos de cumplimiento de los derechos laborales aquí y en el extranjero y también de cumplimiento de los derechos medioambientales y además que asuma una cosa muy clara que es lo que defendemos nosotros por aquí que los bienes comunes

global aquí y fuera por tanto

y fuera y también exigimos al gobierno vasco que ponga pie en pared y de una forma u otra consiga una compensación por los cobros indebidos

y sí también a que sin criminalizar a nadie porque no lo estamos haciendo pero que

de las empresas que tienen sede en euskadi se vele por ese cumplimiento estricto de los derechos humanos laborales y medio ambientales tenemos una herramienta preciosa en cataluña para poder

aprender y poder ponerla en marcha en euskadi porque necesitamos instituciones comprometidas para limitar

gracias señora presidenta señorías bueno han podido ver una demostración de cómo cuando una iniciativa no tiene recorrido

sacar el misal de diario y señor otero señor martínez creo que han reconocido ustedes mismos que

señor otero en la interpelación que he tenido que releer varias veces para saber exactamente cómo compaginar lo que usted decía con lo que

que no sabemos no hila nada o sea es bastante complicado mezcla distintas variables de modelo energético con determinadas prácticas de una empresa que está en sede judicial y que de momento no hay nada aprobado de toda la relación de acciones

podemos resumir que todo lo sentenciado a día de hoy es favorable a la empresa

un caso judicializado sin resolver usted no vela una interpelación y la interpreta

demagógico esa es mi interpretación porque francamente no es posible entender todo lo que usted dijo aquí

no ha reducido la dependencia energética vasca no se han extendido las renovables

es el que más impedimentos pone en el mundo del autoconsumo esto sencillamente y hay exposiciones en esta cámara es mentira y además

pues creo que no lo vuelva a repetir no sé a mí

tampoco me gusta mentir por lo tanto no sé a qué viene como le decía este es un asunto

que es al que me refiero que es al que se refería la iniciativa que está en sede judicial

ustedes desde luego contribuyen y han contribuido al nulo

renovables eso ha sido así y tengo la impresión que van a seguir por el mismo camino contribuyendo al nulo desarrollo de las energías renovables

hablaba en la interpelación de una iniciativa que presentó

y yo le voy a decir lo que decía el señor matute el señor larreina que no sé si son de su grupo o no pero hoy están en el entorno de sus filas decía el señor matute respecto a iberdrola porque aquella iniciativa venía de una posible opa sobre iberdrola y este parlamento cerró filas en torno a una empresa vasca

al margen de la pelea que se esté dando no sean los consumidores los que pagan las consecuencias de dicho debate y que sea la compra de uno u otro sentido o si se mantiene como está que es a lo que nosotros nos gusta dos mil ocho

que la conocemos señor larreina decía importantísimo mantener la sede en el país vasco insistía en apoyar a iberdrola además clamaba por crear una entidad financiera vasca

no sé si lo comparten pero me gustaría saberlo y decía

habló largo y tendido como ustedes e insistía cada párrafo

sí está para leerlo apoyar los proyectos industriales como base de una economía fuerte sí

sí oiga y qué nos presenta qué moción nos presenta usted qué moción nos presenta usted primero

porque ante unas denuncias de ese tipo yo desde luego no voy a opinar

jugoso es crear un centro público esos que ustedes llaman chiringuitos los que ustedes llaman chiringuitos es lo que proponen crear un centro público evaluar los efectos de internacionalización de las empresas vascas y en este centro estarían los movimientos sociales las organizaciones no gubernamentales expertos en derechos humanos sindicatos agentes de la economía social economía solidaria el ararteko

y va a ser el uno por ciento del chiringuito

dónde está la preocupación por la energía oiga en esta moción

dónde está eso que ha dicho usted aquí que estamos vamos también lo decía en la interpelación

que hacemos el ridículo en nuestros porcentajes de renovables

en el noventa y nueve coma nueve por ciento efectivamente y además

seguir contribuyendo esa es su estrategia porque si no lo tenían que haber puesto aquí cuál es su estrategia energética cuál es su posición en el tránsito energético

eso es lo que utilizan ustedes como espada contra el gobierno y contra

la iniciativa del gobierno en este campo es su oposición y lo hacen con las renovables hombre por favor un poco de si de verdad les interesa

contribuyan presenten un modelo de transición energética medidas

el señor martínez pues igual ha sacado el ventilador ha hablado de todo se está desarrollando señor martínez

iberdrola aporta a ese bono social igual que otras

sabe usted que las compañías no podrán cortar la luz en caso de impago sin avisar antes a la administración que informará si se trata de una familia vulnerable o no

actualizarán estos listados semanalmente hay listados ya semanales de lo que permitirá a las administraciones responsables de los servicios sociales identificar

en riesgo de exclusión social y activar las ayudas contempladas para evitar el corte se ha creado además la figura de hogares vulnerables

y las comercializadoras eléctricas deberán contribuir al pago de estas facturas

pero algo se está haciendo y algo hemos avanzado y yo señorías les digo por qué no les interesa a ustedes la eficiencia energética

al alcance de todos los países de todos los gobiernos de todas las administraciones que cuanto menos gastemos mejor el recurso más barato y más eficiente ese que no consume no genera gasto energético eso sí que es

barato en energía hay una máxima obligatoria y es mantener el triángulo energético sostenibilidad económica

siete días a la semana ese suministro mes a mes y año a año recuerden que en españa teníamos nueve mil millónes de déficit tarifario ya no existen ya no son un problema

endeudamiento nos garantiza rebajar la factura eléctrica

político económicos como se dieron en otros momentos tenemos que afrontar la transición energética con rigor transición que debe ir acompañada

adelantarnos ser pioneros y luego pagar

por avanzar le puedo hablar de las renovables

no se va a corregir pero usted sabrá que ha habido tres subasta de renovables que la última

sin la modificación que hizo el gobierno anterior nos hubiese costado trescientos millónes de euros y que hubiese ido a pagar el recibo de cada de los consumidores

por lo tanto creo que se están haciendo avances importantes en el autoconsumo decía usted que en españa somos el estado que peor no sé cómo lo decía

decía que somos el estado que más impedimentos pone en el mundo al autoconsumo mire hay estados

y segundo hay estados que el autoconsumo lo tenían regulado

regulando en españa porque había un déficit y usted lo sabe por lo tanto

nosotros venimos a hablar de cosas positivas de cómo avanzar en la transición energética de qué medidas

poner en marcha con un acuerdo máximo mayoritario y ustedes deberían de estar

si realmente están preocupados por los objetivos que debemos cumplir que todos nos hemos comprometido yo espero esa propuesta

primero escriben una cosa en la iniciativa que llevan al registro

a la señora tapia y hoy nos habla de otra metiendo temas que no tienen nada que ver

ni con nada entonces es muy complicado por tanto puede que mi intervención igual

pero yo ya del problema que hay en colombia de venezuela de méxico y de todo esto pues mire ni un párrafo porque es que entiendo que ustedes mezclan aquí todo no sé muy bien para qué porque lo que en el fondo creo que ustedes traen iniciativas y cuando ve que no hay un acuerdo que no tienen posibilidades de ganarla

para acusarnos a los demás de cosas tan agradables como los colegas de los negocios

defensores de los derechos de los ciudadanos solo a ustedes les preocupa los derechos humanos lo laborales y los medioambientales

con la vulneración de derechos en países como colombia muertes de ciudadanos

no sé intentaré hablar de lo que creía que veníamos a hablar porque con ustedes verdaderamente ya no es que sea complicado debatir es que muy complicado llegar a acuerdos y lo vemos debate tras debate entonces el señor otero nos hablaba de lista de excesos

máquinas de beneficios vulneración de derechos campañas de propaganda

y otra parte que tapamos y disfrazamos la política para que se beneficien unos pues mire señor otero no es que no es verdad es que ustedes utilizan

para manipular opiniones para mentir sobre lo que ocurre en los tribunales

y digo esto porque por una parte aquí estamos debatiendo dos asuntos que tienen una preocupación parece que común

pero que tienen dos objetos diferentes porque a mí me sorprendía la acumulación de estas dos iniciativas porque creo que no hablaban de lo mismo claro escuchándoles hablaban de los mismo y de mucho más

su interpelación señor otero hoy le he vuelto a escuchar con muchísimo interés y usted no deja de sorprenderme le digo

de dos mil ocho por cierto aprobada por unanimidad no sé si le parece un detalle importante por unanimidad en este parlamento que es el parlamento más dividido y más difícil de llegar a unanimidad del mundo aquel día por unanimidad se llegó al acuerdo y quería comenzar de la misma forma que lo hizo el otro día la señora tapia el tema que nos traen ustedes hoy aquí es un tema que está en los tribunales creo

un tema que no tiene sentencia que por tanto quienes creemos en el estado de derecho esperamos a lo que los tribunales hablen y a partir de ahí respetamos lo que digan

nos guste o no y de momento los tribunales en esto no han hablado a día de hoy conocemos dos sentencias favorables y una suspensión cautelar de una multa

no del partido socialista ni del pnv ni del gobierno ni de no sé quién no no de la audiencia nacional

y otras veces ustedes quieren esconder las sentencias son de julio de dos mil doce y de febrero de dos mil dieciséis no del mil novecientos veinte

estos datos por dejar claro el contexto porque oyéndoles a ustedes primero hablamos de temas diferentes y vivimos en mundos diferentes porque desde luego al grupo parlamentario socialista le parece importante e interesante

sea capaz de exportar fuera de nuestra muga a ustedes no porque ya si salen ya la internacionalización es negativa

de lo que le ocurra a los sindicalistas en colombia nada más y nada menos siendo un país de dos millónes de habitantes fíjese si ustedes creen que tenemos influencia

plantean la creación de un centro público para evaluar los efectos de la internacionalización de las empresas vascas tal como le decía la señora lópez de ocariz viene de la mano

el día criticando la creación de organismos de aumento de presupuestos

chiringuito cogiéndole de jerga más de eh bildu

y que desde luego nosotros estamos muy lejos de compartir el señor martínez en su iniciativa nos planteaba primero que desde el gobierno hay una falta de control

es un sistema público en el que se miran muchas comunidades autónomas y hay control hay control de las ayudas que se dan para el pago de facturas energéticas

y también a través de la ayuda de pobreza energética que gestiona cruz roja entonces ese informe que usted el señor martínez dice que a usted le parece tan importante no sé si sabe que de forma trimestral

los ayuntamientos informan al gobierno vasco de cuál es la cuantía que han dado en concepto de ayudas

ayuda al a vivienda ayuda a la energía por tanto creo que el gobierno vasco tiene un control porque aquella administración que gestiona la ayuda informa a quien da el presupuesto de que aquello se está haciendo y cómo se está haciendo y luego nos propone en el punto de la cuantificación de los cobros

porque cómo cuantificaría podemos los cobros según ustedes indebidos por parte de las compañías sancionadores porque desde luego defender los intereses de los ciudadanos

trabajar por una competencia dentro de los marcos de la legalidad es nuestra obligación como representantes públicos

pero que a la hora de ponerlo en marcha ya me gustaría que usted nos dijera cómo quiere gestionar esto

y usted señor otero también sabe que ni el precio de la energía ni la energía en el sentido más amplio de la palabra es competencia del gobierno vasco lo saben y vuelven a traer este tema lejos de proponer soluciones lejos de traer el esquema del cambio del sistema

a la misma empresa por cierto por cierto una empresa que

una empresa que parece que a nivel tributario puede acabar siendo importante en alguna de las haciendas digo yo no sé si podemos prescindir así tan abiertamente de iberdrola y de otras empresas de las que usted no no porque es que las acusaciones que ustedes hacen de esta empresa

entonces de momento que los tribunales hablen y después de todo esto

yo planteaba propuestas en positivo entonces para nosotros los socialistas

de la eliminación del impuesto del sol y la reforma del último decreto de autoconsumo energético de la relación de la revisión de la relación consumidor

del incremento del ritmo de cambio de los contadores de la modificación de la tarifa eléctrica hay un montón de temas de los que creo que en positivo debiéramos de ponernos a hablar si lo que queremos es solucionar este problema porque creo como les he dicho en muchas ocasiones que el tema del debate energético está sobre la mesa y convendría que lo hiciéramos de una forma pues más responsable

es un asunto que preocupa y ocupa a la ciudadanía a toda la ciudadanía y creo que debiéramos de trabajar en aquello que podemos

y por concluir con alguna de las cosas que han dicho ustedes en su primera intervención diré que cuando un gobierno va a un viaje oficial en este caso a intentar a hablar de las empresas vascas fuera de nuestras fronteras es positivo

es positivo no hay que ver la internacionalización de nuestras empresas siempre como algo negativo no se puede mezclar con procesos políticos que están muy lejos de los que ustedes han traído hoy a hablar están ustedes muy acostumbrados esta legislatura

por qué no han presentada enmienda querrá decir que vamos a votar en contra pero cómo no vamos a votar en contras si primero es muy difícil entender lo que proponen si yo leo

y primero ya digo que no entiendo por qué lo hemos acumulado porque creo que no hablan de lo mismo excepto iberdrola que es la parte común pero es que es muy difícil llegar a un acuerdo cuando escriben una cosa

es que es muy complicado llegar a acuerdos energéticos en temas energéticos con ustedes porque en el fondo huyen del debate real señor otero y señor martínez

de los derechos de los ciudadanos por supuesto que hay que blindar los derechos de los ciudadanos por supuesto que hay que pensar todo lo que podemos beneficiar para que a los ciudadanos no se les incremente cada vez más la factura de la luz y tengan derecho a pagarlo por supuesto pero aquí se han ido creando medidas el tema de la pobreza energética y decía el señor martínez es que el gobierno debiera dialogar con iberdrola es que ya lo hace señor martínez

ayuntamientos como el ayuntamiento de bilbao se está intentando mediar con las empresas que dan la energía

el uno de junio igual de hace cuatro años que es que hay muchas cosas que este gobierno ha hecho y muchas que le quedan por hacer pero creo que nos harían un favor a todos para intentar acordar algo y dejar de perder el tiempo en muchos debates escriban lo que defiendan

mezclar lo que dicen que les preocupa de iberdrola con sentencias judiciales que no existen
y se pueden poner como quieran pero pierden todas las iniciativas eskerrik asko rojo

muy claro qué decir no sé si hablar del título de las mociones de lo que está pasando

de que en los dos casos anteriores parecidos a este los temas se han quedado resueltos a favor de la empresa

está en este momento invalidada por la propia audiencia nacional no sé si hablar

a eh bildu por la audiencia nacional y por la guardia civil no sé si hablar

no sé si hablar de las ayudas de pobreza energética no sé si retomar debates anteriores que hemos tenido en esta cámara que tendrían que ver pero que ya

a pesar de que no les guste demasiado lo que vayamos a decir en primer lugar señor martínez zatón en el punto uno nos implica o nos pide

pero si esto lo hemos pedido hace dos meses y lo firmamos ustedes

pero luego dice hay que cuantificar los cobros indebidos por parte de las compañías eléctricas sancionadas en dichos periodos pero si corre usted más que la audiencia nacional en este caso

esta multa aquí hasta que desembaracemos de alguna manera toda esta maraña porque el problema no está en quién altera o quién no altera el sistema y de eso también hemos hablado en estos últimos meses aquí el problema está

será complicado que lo podamos ver de una manera

nítida pero es que da la sensación de que aquí no se hace nada y si vamos a esa moción a esa proposición no de ley a la que me estoy refiriendo veremos uno que sí se están haciendo cosas dos que lo que usted pide aquí

tres que si los precios se incrementan se incrementan para todos no solo para esta compañía y cuatro que de ser esto así que si en un momento determinado

no creo que sea el gobierno vasco el único que tenga que intervenir ya se lo han mencionado

el ayuntamiento de bilbao podría intervenir la diputación de gipuzkoa

pero no creo que sea función de esta cámara determinar cuáles son los veredictos de la audiencia nacional

por mucho que la audiencia nacional ahora como es enemigo de nuestro enemigo sea

por lo tanto como digo complicado la proposición de bildu

y prepárense la intervención en base a este texto que es lo que he hecho yo

dice mire en el primero podríamos estar en parte de acuerdo el parlamento expresa su preocupación ante la denuncia interpuesta por la fiscalía anticorrupción pues claro claro que estamos preocupados también

estamos y estaríamos preocupados siendo cualquier empresa vasca que no sea iberdrola y estamos expectantes a ver

puede tener muchas más implicaciones para todo el mundo no solo para el gobierno vasco como decía el señor martínez zatón sino para cualquier usuario

en el segundo punto dice el parlamento rechaza múltiples conductas y prácticas que la empresa iberdrola y en general las empresas transnacionales emplean en sus procesos de internacionalización

pues no hubiese estado de más que nos dijese cuáles para rechazarlas directamente escrito de esta manera parece y es lo que yo interpreto

en contra de la internacionalización de las empresas de este país y ya si vamos a la segunda parte tela que frecuentemente se llevan a cabo sin ningún control público y van en contra de derechos humanos fundamentales oiga mire yo no conozco

ni uno sea pequeño mediano o grande que diga ahora voy a internacionalizar la empresa

y no quiero calentar el debate al revés quiero intentar sosegarlo pero de verdad que cuando en la misma frase leo empresarios vascos y conculcación de derechos fundamentales no tengo que irme a colombia no tengo que irme a bolivia basta con estar aquí

y en tercer lugar el parlamento insta al gobierno a que presente en el plazo de seis meses una propuesta para la creación de un centro público para evaluar los efectos que conlleva la internacionalización de las empresas vascas

las empresas vascas son todos menores de edad no tienen leyes

instalan en alemania en estados unidos donde por cierto también iberdrola ha despedido gente etcétera

las empresas vascas van a arrasar a arrasar con países débiles que no tienen legislación oiga pues no lo sé y luego se nos dice

que el lehendakari va a una misión comercial y no se lleva

no va hablar de derechos humanos solo va hablar de economía pues oiga me recuerda mucho

aquella misión comercial también del año dos mil doce

a uruguay en la que viajaron

el diputado general de gipuzkoa martín garitano oiga y no veo ni a ela

veo al director del ramo veo que fueron con veinte empresas vascas tratando de crear oportunidades de negocio con empresas uruguayas

porque aquí según quién haga las cosas cambian completamente cinco días se reunieron fíjese usted con las principales empresas la petrolera ancap la eléctrica ute y la de ferrocarriles

así como con las máximas autoridades uruguayas ni derechos humanos ni sindicatos

pero como lo hizo la diputación de gipuzkoa por lo visto santo y bueno de verdad que es muy difícil

pero a qué vamos a enmendar al título al texto o a lo que hoy nos ha contado usted aquí

con un texto que deja a entender que estamos en contra de la internacionalización o que los empresarios y las empresarias de este país

son malos y se dedican a ir por ahí de correrías

los derechos humanos pues es difícil llegar a ningún acuerdo no obstante yo le manifiesto antes le hablaba la señora goirizelaia

en álava también solemos decir fuste cuando traigan algo con fuste tengan claro que la mano del partido nacionalista vasco está abierta para hablar de temas

que tengan que ver con la energía en el caso de hoy he empezado la intervención hablando de que tocaba hacer un poco de

de txirrita o mejor dicho voy a terminar con medio

moción que usted nos ha traído aquí no leo la primera mitad por respeto a la cámara pero respecto a la segunda egon lasai zure mozioarekin otero jauna

y lo han dicho aquí no saben de qué hablar y es lógico porque yo creo que cómo es oyen pero no escuchan o escuchan pero no oyen yo creo que

quedó claro que había un montón de hilos de los que se podían tirar y evidentemente cuando después uno trae una moción no puede tirar de todos esos hilos a la vez porque si no parece una ensalada

es vamos a hacer algo en propositivo y vamos a ver que el hecho de que

está generando problemas en otros países vamos a ver si le ponemos un poco de freno control democrático etcétera etcétera etcétera es curioso que ante esto ustedes digan que no entienden la propuesta no sé qué es la parte que no entienden

sobre lo que ha dicho la señora de ocariz poco voy a decir tengo la sensación

de presentar nuestras propuestas y nuestros discursos como si fueran

no podemos decir mucho más evidentemente nadie en esta bancada está hablando de la negación a la internacionalización o el apoyo a las empresas en ningún momento se ha dicho eso no sé por qué lo dicen lo que estamos hablando es de mecanismos de control democrático

no entienda bien de lo que estamos hablando con respecto a lo que se dice a lo que ha dicho la señora rojo del partido socialista hay algo que sinceramente ya me está bueno no sé si me está enfadando o no sé lo que está pasando porque me da la sensación de a veces

tenemos boca estamos aquí hablamos no otra cosa es tener legitimidad en lo que se dice

le voy a contestar más que a través de mikel otero de euskal herria bildu le voy a contestar a través de su propio secretario general

acaba de ganar unas primarias en base a un programa que ha presentado el programa que ha presentado

de poner coto al poder abusivo de los oligopolios dice el poder desproporcionado que han ido alcanzando las grandes empresas tanto en españa como en otros países

las infraestructuras bancas seguros dice uno de los compromisos más importante del socialismo democrático

debe ser trabajar para controlar el poder de los oligopolios neutralizando

en las regulaciones públicas su elusión de impuestos a través de paraísos fiscales etcétera etcétera y dice para ello en primer lugar será necesario poner en funcionamiento

pero no haremos ninguna concesión a los poderes abusivos que operan hoy en él con esta propuesta esta propuesta

encima de la mesa y apoyada por la mayoría de sus bases explíqueme usted a ver en qué no coincide con nuestras propuestas de control democrático de la internacionalización de las empresas porque en realidad yo ya no sé si usted habla en nombre del gobierno vasco

o no entiendo nada o no entiendo nada de lo que estamos hablando eta amaitze aldera

porque claro hablamos de iberdrola y nos metemos en la concha y parece como que si

acerca sobre la mayoría de edad o no de los países y de los pueblos a los que van estas empresas

repsol lo primero que hizo fue amenazar el estado argentino

tenía posibilidad de demandarle en los tribunales ordinarios argentinos

tenía posibilidades de denunciarle frente a un tribunal de nueva york en base de un acuerdo de inversión

de denunciar al estado argentino en madrid en un tribunal mercantil el pueblo mapuche que lleva décadas sufriendo

rica en hidrocarburos sabe usted dónde tenía la posibilidad de denunciar a repsol

y sabe qué posibilidades tenía usted o yo o cualquiera de denunciar las actitudes de la empresa española repsol por las tropelías que puede cometer en argentina o en otro país ninguna ninguna así que lo que proponemos es que se cree un centro para ver qué medidas tenemos que tomar y tal vez de ahí entendamos que tenemos que desarrollar una ley o lo que sea pero ustedes no están dispuestos y lo que estamos hablando es de control democrático de las empresas

eskerrik asko yo la verdad que

a ser el nuevo que me llamen el nuevo pero es que la transacción que hemos hecho es la

de lo que se está debatiendo el mismo texto excepto dos palabras en la parte de nuestra proposición

no sé haber venido preparados yo qué quiere que le haga o sea es exactamente lo mismo o sea no hagamos demagogia sobre eso señora lópez de ocariz es verdad que las empresas

de la proposición de pobreza energética que por cierto llegamos a un acuerdo tampoco es tan difícil

lo que decíamos es que los poderes públicos no tenían que

las empresas por esa tan cacareada responsabilidad social corporativa que no hay quien se la crea pero que lo hagan por ahí

para poder abordar los problemas que tenemos con este tipo de grandes corporaciones porque el problema no es iberdrola nadie está cuestionando ese tema

este tipo de prácticas y es lo que hemos dicho hasta ahora tampoco el problema es la internacionalización así dicha solo con ese nombre sino que estamos hablando

de ese proceso nadie está en contra de eso y en ningún momento de la iniciativa está referido

ese tema porque a mí me parece que no hay voluntad para ni siquiera dialogar con iberdrola

facturas pero respecto a un tema interesante que introducía

y derechos humanos también más de una vez que es lo del centro de evaluación de las entidades de las empresas vascas en el exterior

hay una propuesta aprobada en cataluña que se va a poner en marcha este año no sé si chiringuito por parte del partido popular y parece que es refrendado por el partido

parlamentario del parlamento de cataluña del partido popular de cataluña defendía

un buen instrumento no un chiringuito ni siquiera una ideaca para que el parlamento podría citar a comparecer a los responsables de las empresas cuando denuncias bien fundamentadas sobre sus prácticas

parlamentario del partido socialista de cataluña que dice que este instrumento tiene que servir

también en nuestra casa predet dice también en estas declaraciones que también puede ayudar a evitar el dumping social pues no sé póngase de acuerdo con sus

cataluña por lo menos no utilicen calificativos de chiringuitos y de ideas no efectivas cuando el propio sistema de naciones unidas está debatiendo acerca

ya veremos qué opinan pero bueno si no quieren poner en marcha nosotros vamos a

en que se ponga en marcha también en euskadi porque además señores del partido nacionalista vasco desde la agencia vasca de cooperación se están financiando iniciativas sociales que van en el mismo sentido pues si no sabemos ni lo que financiamos

y que están haciendo además una labora esencial y primordial en este sentido

cuando los tribunales terminen toda la instrucción ya le preguntaremos tanto al partido nacionalista vasco como al partido socialista de euskadi como al partido popular si hay voluntad de

poner los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses empresariales y además de la multa por qué no exigir a estas empresas que tengan una responsabilidad con los sitios en donde operan en este caso en euskadi porque estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas vascas estamos hablando de los presupuestos

vascos por tanto traeremos otra vez el debate si la sentencia se demuestra desfavorable para los intereses

lo que harán ustedes con la recuperación o no o con compensaciones o no de las actividades de este tipo de empresas insisto el problema no es iberdrola no manipulemos nadie está

sino la aplicación de criterios de derechos humanos sociales laborales y medioambientales en esa internacionalización

en ello para que en los siguientes debates por lo menos convencer
a algunos de ustedes para que podamos aprobar estas iniciativas eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

brevemente por aclarar algunas cuestiones porque es verdad que estamos en posiciones tan dispares que difícilmente

ni una sola mención acabo de releer su interpelación a un centro público de control

repase lo que dijo porque yo no lo he encontrado y tengo la traducción del euskera por lo tanto de eso no habló

por lo tanto yo le digo que usted trae aquí una moción que no hizo mención en la interpelación y luego el discurso que usted hace aquí

o del centro de control este claro llaman centro

de lo que hagan nuestras empresas fuera un centro de espionaje eso es lo que ustedes quieren y además espiado por sus amigos

oiga usted sabe que estamos en un mundo globalizado y que

a euskadi y si contribuimos todos más más

ese es el objetivo porque usted qué va a hacer ante

una empresa que se abre en donosti que el centro de control está en ámsterdam y se diseña desde un país de oriente usted

o no qué quiere hacer cuál es el control yo creo que tenemos los estados

y los ayuntamientos y las diputaciones y esta comunidad autónoma para saber y para controlar que las actividades se desarrollen dentro de un orden

que será mejorable pero un centro de control

termino de entender de verdad es que ustedes quieren controlar a todo aquel que sale fuera

ese proyecto que te han adjudicado no lo hagas

a qué proyectos se tienen que presentar nuestras empresas a qué comercios tienen que acudir a qué ferias tienen que acudir cómo tienen que ir eso quieren decidir ustedes no lo entiendo no lo han explicado ustedes quieren un chiringuito

punto no quieren más no han explicado qué va a hacer ese centro qué va a hacer el centro eso es lo que quieren ese es su compromiso

luego se habla de garantizar los derechos públicos pero las empresas no tienen que garantizar los derechos públicos será la administración

las empresas no creo que tengan que garantizar los derechos públicos para eso tenemos una administración que es la que le corresponde luego veremos cómo lo hace

la administración y nos decía que nuestro compañero

en el parlamento pues claro en este parlamento también comparecen empresas si se les llama comparecen por lo tanto estoy de acuerdo con mi compañero de cataluña que comparezca iberdrola en el parlamento pues

de verdad yo creo que ustedes hablan de internacionalización de las empresas lo que quieren es el control de las empresas mayor control eso no contribuye para nada

en esta comunidad autónoma es que se cambian se trasladan a otro sitio y se van fuera de ese control que ustedes quieren hacer que es lo que está pasando en cataluña

se van claro que se van por qué porque ya están hartas muchas empresas de controles de pegas de obligaciones por lo tanto

usted que este órgano que ustedes proponen va a contribuir a aumentar nuestro tejido empresarial y a aumentar la potencialidad de nuestras empresas en el exterior

demuéstreme que eso puede ser así no lo ha hecho aquí por lo tanto

sí gracias presidenta y acababa el señor otero su intervención diciendo no mezclen por mezclar hay que tener valor señor otero no mezclen por mezclar y usted incluyo al señor martínez porque también le vale la frase

hablan de vulneración de derechos mezclándolo con las empresas vascas hablan de viajes oficiales como le digo le invito a que le pregunte al señor lehendakari cuando vuelvan

es de la preocupación energética y del abuso de los precios a los ciudadanos señor otero pues usted mezcla y todo

en estos vocablos populares que dice

han visto que no que les hemos explicado perfectamente por qué votamos no

y han utilizado nuestros argumentos para utilizarlos como su propia justificación eso es lo que ustedes han venido a hacer y luego tienen el valor señor otero

una invitación señor otero de decir el programa que plantea el señor sánchez que

que tenemos un congreso entonces es que hay que aprobarlo probablemente se apruebe tal y como viene

lea todo y no lo que le interesa porque lo que usted ha leído está dentro de un epígrafe que dice economía colaborativa social y solidaria y ese párrafo que usted ha leído tenía otro debajo que lo que hablaba a lo que usted se refería era al nombramiento a la independencia

sean profesionales y no se manipule y además ese párrafo acaba diciendo no estamos en contra del mercado pero no haremos concesión a poderes abusivos eso es lo que dice el programa del señor sánchez secretario general del partido socialista obrero español entonces no lea lo que le interesa léalo todo

del proyecto político de un partido que es lo que usted ha venido a hacer también le digo no me sorprende que no entienda lo que proponemos

sentados allí eso es lo que pasa que otra vez ha querido aquí venir a manipular y lo peor ha creído que me iba a pillar pero es que yo ya señor otero es difícil que usted me pille a mí en la tribuna porque señor martínez me preparo mucho los temas

por tanto usted no venga aquí a decir que nos preparemos los temas que venimos a decir que no sabemos el qué

mesedez que me leo la hemeroteca que sé lo que dijo el señor lópez en el dos mil ocho que sé lo que dijo el señor

porque estaba aquí y porque me preparo los temas y me los leo y me los leo señor otero

usted no sabe ni el documento propio ni la forma de aprobarlos y parece que no sabe ni que tenemos congreso que tiene que decidir si ese documento va para adelante pero el documento dice lo que dice

y dice y usted en nombre de quién habla pues mire ambiciosa es una en nombre del grupo parlamentario de los socialistas vascos

y en nombre de uno de los partidos que forma coalición del gobierno vasco le parece poco le parece poca legitimidad le parece que no tengo derecho a decir lo que digo y usted me habla a mí de legitimidad usted

ni a la altura del tobillo mucho tiene que andar todavía usted y eh bildu

y de cosas que no son energía o sea que por ahí no vaya por ahí no vaya porque usted ha empezado diciendo que no sabemos de lo que hablamos y que por eso décimos lo que décimos

me contengo imagínese todo lo que podría decir que me callo por respeto a esta cámara y porque a una le gusta mirar para adelante después de prepararse los temas señor martínez y decía el señor martínez no hay voluntad política de dialogar con iberdrola desde dos mil quince iberdrola ha firmado cincuenta convenios

para proteger a clientes en riesgo de pobreza energética eso a nivel estatal

a estos señores no a ustedes no lo sé porque a veces sí y a veces no y a veces medio pensionistas

cruz roja en euskadi e iberdrola firman un acuerdo para agilizar y facilitar la forma de pago de las personas usuarias

y o gas es voluntad política de iberdrola de este gobierno

porque claro creo que ustedes vienen aquí y viven en un mundo

o se lo quieren inventar pero es que lo peor es que faltan a la verdad manipulando las cosas

en temas que afectan directamente a los ciudadanos y eso es peligroso e irresponsable y como me quedan ocho segundos le diré señor otero dentro de dos semanas es el congreso de mi partido en madrid si usted quiere ir

hace congresos no solo con afiliados sino con simpatizantes veo que le interesa tanto el documento

igual así se entera de lo que el partido socialista propone para la energía y deja de manipular y como les digo a esta parlamentaria

el problema es la internacionalización usted consulte el diario de sesiones el problema no es iberdrola es la internacionalización

y después el señor otero nos dice voy a poner otro ejemplo porque parece que solo hablamos de iberdrola nos metemos en la concha y digo habré vuelto a leer mal pero es que sigue hablando de iberdrola

por lo menos los títulos de ambas propuestas y termina diciendo que no mezclemos por mezclar cuando hemos hablado de repsol

tendrá que ser así entonces yo para que me vaya centrando ya que va terminando el debate

veníamos a hablar de relaciones exteriores de empresas vascas y de conculcación de derechos humanos

qué tiene que ver en esto los problemas legales de iberdrola que es lo que encabezaba la moción

porque hemos pasado como digo a las relaciones exteriores en fin en cualquier caso yo voy a insistir en lo positivo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que el mercado que fija el precio de la energía es poco transparente y hay que reformarlo eso aquí es poco transparente hay que reformarlo para que no se den este tipo de problemas que está teniendo

luego ya veremos a dónde llega la audiencia nacional y a partir de ahí

que por parte de mi grupo el señor aguirre controla mucho más como es el del derecho internacional los ordenamientos jurídicos propios de cada uno de la países en los que puede haber

como locos estas y otras a conculcar derechos dice el señor otero

porque hemos leído el parlamento rechaza múltiples conductas y prácticas que la empresa iberdrola y en general las empresas trasnacionales sin ningún tipo de acotamiento todas

emplean en sus procesos de internacionalización que frecuentemente se llevan a cabo sin ningún control público

y aquí en este pequeño país que todavía no es soberano para tomar sus propias decisiones

un organismo internacional que se encargue de velar por lo que no velan los propios gobiernos a donde van nuestras empresas yo de verdad

mucho más lógico el camino que está tomando naciones unidas y al que espero en defensa de esos derechos humanos que es verdad muchas veces se ven conculcados por empresas trasnacionales por grandes empresas trasnacionales

emporios internacionales sean protegidos por el derecho internacional y también

por el de los estados a partir de ahí

seguir animando al gobierno en que siga en su determinada apuesta por la implantación de modelos de gestión empresarial en los que la transparencia sea precisamente un aspecto a reforzar y valorar en el conjunto de las empresas vascas como digamos una de las pautas de gestión avanzada que espero y deseo nuestras empresas vayan adquiriendo y en segundo lugar también

de que la internacionalización de nuestras empresas redunda en el bienestar de la ciudadanía vasca y estoy convencido también de que la internacionalización de nuestras empresas más allá

y de crear puestos de trabajo en otros países proyecta también nuestra identidad

y creo además que la gran mayoría de nuestras empresas contribuyen a la configuración de un nuevo orden internacional más justo

y al servicio de las personas por eso insisto no generalicemos eta bukatzeko badakit denbora agortu zaidala

eta zer esan unibertsitateetan karrera egiteko zailtasunez creemos que de la visión idílica de la investigación a la realidad hay un salto radical

se disputan en un número cada vez mayor creciente de aspirantes

de investigador vacante la competencia es feroz y hasta unas pocas décimas pueden marcar la diferencia que qué son esas décimas son líneas en el currículum

hay una presión constante por publicar una competición que también provoca el abandono de muchos jóvenes investigadores vocacionales además la de la investigación es una actividad que suele consumir mucho muchísimo tiempo horas y horas

de análisis de redacción y de correcciones tiene un coste muy alto pasar largas temporadas en el extranjero y siempre con jornadas que se prolongan horas y horas

pero que resulta muy complicada trasladar al papel y cuántas veces además hay que trasladarla en inglés

de los y las investigadoras donde durante su etapa predoctoral y postdoctoral siempre con la promesa de conseguir un puesto estable en un futuro se trata de auténticos contratos implícitos en los cuales los afectados intercambian una posible seguridad laboral a futuro con unas condiciones

tiene otras desventajas por el especial carácter y condición de la relación entre el director de tesis y el doctorando además antes de alcanzar un puesto estable es muy frecuente que investigadores que desarrollan el mismo tipo de trabajo lo hagan en condiciones laborales muy distintas esto es una realidad aquí en la upv tal y como nos lo contaron en la comparecencia pueden por ejemplo coexistir en un mismo centro y realizando el mismo tipo de actividad investigadores con beca y con contrato que cobren en negro sin ningún tipo de vinculación en organismos que cobren mediante dietas o pago de colaboraciones externas

normalmente porque están esperando la concesión de alguna ayuda el trabajo de la mayoría de los investigadores predoctorales y de muchos postdoctorales

un porcentaje muy reducido ha disfrutado de un contrato con los efectos a futuro que esto tendrá otro gran problema de los investigadores becados contratados por proyectos o por programas de ayudas a la contratación ha sido también la ausencia de derechos y de representatividad

derechos básicos derivados de su actividad profesional como por ejemplo revisiones médicas inclusión en programas de prevención de riesgos laborales o representación en diferentes órganos

bien egun on en el anterior debate me ha parecido entender a la representante del partido socialista que esta cámara o este parlamento era el parlamento donde más difícil o el parlamento del mundo donde más difícil es llegar a acuerdos y la verdad es que me ha llamado la atención porque yo

o yo tengo la sensación de que en este parlamento se llegan a muchos acuerdos lo cual tiene indudablemente su valor positivo pero también sus cuestiones negativas en tanto en cuanto te dejes cosas que para un grupo político puedan ser muy importantes en aras

y con este punto nosotros hemos firmado hoy la transacción pero no podemos ocultar que no estamos en absoluto satisfechos

porque nos parece que se quedaba muy corta la hemos firmado y voy a explicar por qué la hemos firmado porque tampoco nos parece

lo que vamos a aprobar pero nos parece que nos quedábamos

que se podía haber aprobado porque además se nos presentó en un primer momento una propuesta de transacción que a nosotros nos parecía más completa

hemos firmado la propuesta y que además no eran contradictorias entre sí por lo tanto pues a nosotros eso pues nos parecía un valor y mucho mejor finalmente por la razón que sea algunos grupos han decidido que era mejor no ir tan allí y nos vamos a quedar con una propuesta

mucho más sencilla a nosotros nos parecía que había dos cuestiones importantes

que se podían haber acordado una la primera en la que sí está incluida en lo que vamos a aprobar

con lo que el parlamento le va a instar al gobierno vasco a hacer

que de momento son pocos los deberes que le vamos a poner hoy al gobierno vasco en relación a esto pero es verdad que esta cuestión sí queda recogida porque sí que le ponemos unos deberes pero había una segunda cuestión

en ese cambio que se hizo en los tipos de contrato que finalmente no ha quedado recogida y que a nosotros sí que nos parecía importante que hubiéramos dicho algo

desde este parlamento nosotros planteábamos en ese sentido

sobre todo pensábamos que la segunda cuestión

era importante por lo que he dicho que era el origen de la iniciativa

pues que finalmente se quede fuera porque pensábamos que corríamos el riesgo de hacer una iniciativa de esas que hemos visto que se han aprobado aquí algunas que son brindis al sol y nosotros finalmente hemos firmado por una razón porque se le ha puesto un plazo al gobierno se le insta un estudio de la situación de este colectivo lo cual está bien y va a ser una herramienta para que entiendo que los diferentes grupos traigamos propuestas concretas para trabajar en este sentido

entendemos que razonable de tres meses y eso es lo que a nosotros nos ha animado a finalmente a firmar la iniciativa pero creemos como decía que se

porque no recoge nada sobre el hecho que motivó

al que hacía referencia porque se decía

eh bildu que el gobierno del estado tenía una falta de respeto para con la ciencia y con las personas científicas y es algo con lo que nosotros estamos de acuerdo y por lo tanto pensamos que se debería haber aprovechado esta iniciativa para dirigirnos también precisamente a ese gobierno al gobierno del estado al gobierno

de esta falta de respeto por la ciencia y también y sobre todo es responsable de la cuestión concreta de ese cambio perjudicial que se hizo en los tipos

a la potente resistencia que se originó por parte de afectados y también de sindicatos entendemos que se debe cuando menos pedir explicaciones y exigir responsabilidades por una decisión injusta cuya intencionalidad aún desconocemos y que afectó a los predoctorales también aquí en euskadi más allá de que estas explicaciones se hayan pedido en el congreso de los diputados por diferentes grupos que tenemos representación en el parlamento vasco nosotros entendíamos

para pedir esas explicaciones en tanto en cuanto afectaban a los predoctorales en euskadi

nosotros creemos que a la tradicional falta de apoyo institucional a la investigación se sumaba la desprotección y la inseguridad jurídica a la que miles de investigadores se veían sometidos cuando se cambió de forma unilateral estos contratos de trabajo

modificando la vida laboral de personas afectadas sin comunicación ni a los interesados ni a los representantes de los trabajadores se les cambió como se ha dicho ya el contrato

ese cambio unilateral conllevaba una importante reducción de los derechos laborales de estas personas entre otras cosas una duración máxima de dos años frente a los cuatro que dura un contrato predoctoral normal los que se venían utilizando

la pérdida del derecho a indemnización por finalización de contrato

en el mismo ámbito en la misma empresa además de serios problemas como es más

para conseguir la tarjeta sanitaria europea a día de hoy todavía no sabemos realmente quién se realizó esa modificación algo que por lo tanto nosotros entendíamos que deberíamos haber exigido también desde este parlamento nuestro grupo no cree que ese cambio

objetivos concretos pero lo único que está claro a día de hoy es que suponía un nuevo paso en la precarización aún más

en el mundo del trabajo en general como en el mundo científico en concreto en esta ocasión cuando en el año dos mil trece desaparecieron definitivamente las becas de investigación

pasando a contratos laborales de cuatro años regulados por el artículo veintiuno de la ley catorce barra dos mil once no se creó un código especifico como entendemos que era preceptivo

la seguridad social optó en aquel momento por asignar como se ha dicho también el código cuatrocientos uno el de contrato

cuatro años tiempo en nuestra opinión más que suficiente para que el gobierno en este caso el gobierno de mariano rajoy hubiera encontrado un encaje adecuado y ajustado a lo establecido en la normativa que se ajustase a la legalidad y que no termine generando desprotección inseguridad jurídica y precariedad

el gobierno del estado no ha hecho nada en ese sentido pero en cambio se le ocurrió modificar de la noche a la mañana a la brava y sin contar con nadie los tipos de contrato

un auténtico despropósito que también nos afectaba aquí en euskadi y por eso ya sé que me repito considerábamos que hubiera sido necesario y posible incluir en la iniciativa pedir esa explicación pedir esas responsabilidades esta modificación que se hizo es verdad ha puesto de nuevo en el debate político algo que sí conocíamos pero que es verdad que estaba como tantas precariedades oculto que es la situación en la que se encuentran los trabajadores del mundo científico falta de estabilidad laboral que supone un hándicap de primer orden para la consolidación de la investigación como motor de desarrollo de país en nuestra opinión es imprescindible que se apueste por el impulso el desarrollo y la innovación como prioridad y no como un lujo prescindible o como una vía de empleados baratos creemos que es necesario para ello acabar con bajos salarios con precariedad laboral con escasez de recursos en un sector el de la investigación

si es lo que queremos y nosotros sí basado en el conocimiento y no en la competición entre las empresas a base de precarizar a los trabajadores que es lo que tenemos

una compañera en situación una compañera de este colectivo predoctoral que había surgido hace poco el debate de los cocineros que trabajan gratis en

de alto standing y que se decía que lo hacen a gusto porque aprenden y tal y ella me decía

por amor a la ciencia una manera visual de explicar

de la ciencia nosotros hemos firmado la iniciativa lógicamente vamos a votar a favor creemos que en ese plazo podremos y con ese estudio traer iniciativas más concretas pero pensábamos que nos quedábamos muy cortos

sobre la barbaridad que se hizo más allá de que se revirtiese eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea pues para comenzar comparto plenamente el diagnóstico que ha hecho la señora

diagnóstico perfectamente acertado y ajustado a la realidad y por tanto lo hago mío

manera nosotros el grupo parlamentario socialista muestra también su preocupación por la situación que está viviendo este colectivo no solo en euskadi sino a nivel

también lo ha dicho el señor hernández que el gobierno dio marcha atrás rectificó y volvió a la situación de origen lo cual no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo

se revirtió una situación que para nosotros era muy grave pero no deja de ser grave la situación que actualmente

ese colectivo y creemos que a la ciencia en general y a este colectivo en particular no se le está dando

el sitio que merece y tenemos que reconocer que tenemos una deuda pendiente

que entonar el mea culpa aquellos que hemos tenido responsabilidades de gobierno y que después

desarrollarla adecuadamente y en esta cuestión y también los partidos que desde la oposición pues quizá no hayan tenido

todos somos responsables yo desde luego asumo la responsabilidad que le corresponde al partido socialista obrero español en este caso y lo hago sin ambages porque además creo que es así creo que en este sentido tenemos que hacer una autocrítica muy profunda porque es una deuda pendiente que como decía no viene de antes de ayer son dieciséis años sin desarrollar algo

trece de la ley de universidades que recoge la necesidad de desarrollar un estatuto del personal docente

ni un solo minuto es de vital importancia desarrollar ese estatuto de una vez por todas entre otras cosas por qué porque la ciencia

indiscutible del futuro de nuestro

sociedad por tanto es una prioridad absoluta

adecuadamente a este colectivo a la ciencia en general y al

en particular es incomprensible que ese personal investigador cuente de alguna manera con un reconocimiento social

reconocimiento laboral que estén trabajando en situación precaria que estén trabajando en una situación de inestabilidad laboral que de alguna manera muchas veces invita sobre todo al colectivo más joven de investigadores

en el extranjero por tanto si ya en el dos mil seis conseguimos que ese colectivo pasara de becarios

yo creo que ya va siendo hora de que cuenten con un estatuto laboral propio que cuenten con unos derechos y con unas condiciones laborales que les dé estabilidad y que tengan certidumbre en cuanto a su trabajo porque como decía anteriormente el futuro de este país depende en buena parte

y de derechos es que es de cajón es una cuestión de sentido común sería imperdonable que muchas de las personas de las designaciones que se viven en otros ámbitos laborales no se reconozcan en el ámbito de la investigación podemos acabar con un plantel de investigadores en situación laboral precaria

en aras de que avancemos en aras de que realmente seamos una sociedad no adaptada a los tiempos actuales sino

tengamos personas no solo formadas sino que tengan un reconocimiento laboral perfectamente definido perfectamente garantizado con una estabilidad que nos permita

garantía por tanto en el presente no podemos perder ni un minuto y yo también hago mía la reivindicación al gobierno de madrid para que se ponga las pilas al respecto nosotros en marzo del dos mil quince registramos y debatimos una moción consecuencia de interpelación al ministro de educación y al de trabajo que en fin

en marcha el desarrollo normativo de este artículo dieciséis de la ley de universidades

se puede hacer se puede hacer mucho independientemente de que el gobierno

independientemente de eso nosotros también podemos iniciar un recorrido diagnosticando haciendo un análisis de cuál es la situación de este colectivo

alternativas caminos soluciones para qué

para ver cómo se les puede contratar en qué condiciones se les puede contratar cuáles son las diferentes etapas las diferentes categorías que puede tener este colectivo este personal en algunos casos docente en otros casos exclusivamente investigador

su futuro laboral también desde aquí desde euskadi si tenemos competencias si tenemos resquicios y tenemos posibilidades de hacerlo para poderlo hacer desde el consenso y desde el diálogo

vamos a tenerlo fácil para ponernos de acuerdo pero más allá de eso también para realizar esa misma reivindicación al gobierno de madrid que sea también el gobierno de madrid el que inicie

diferentes comunidades autónomas sería lamentable como decía que nuestros jóvenes más brillantes tuvieran como única salida la puerta hacia

espero que este sea un primer paso para un gran acuerdo en euskadi pero que también sea una base una piedra para que el gobierno de madrid encienda su luz roja y se ponga ya las pilas no solo a trabajar unilateralmente sino a través del diálogo y del acuerdo no solo con el resto de fuerzas políticas de madrid

zerbait izatera pasa dira bada zerbait a pesar de todo aunque tienen contrato una posible carrera científica por delante y capacidad de asociarse que lo hemos visto

algo que realmente es imprescindible olvidando mi nostálgico pasado muy pasado ya y volviendo al presente que es de lo que se trata emularé

ministro español de defensa en tiempos de un indescriptible presidente de gobierno

y con fuerte viento de levante en una fecha no determinada del mes de febrero del dos mil diecisiete el ministerio de empleo y seguridad social

cambió el epígrafe de los contratos de los investigadores predoctorales del cuatrocientos uno al cuatrocientos veinte es decir

a contrato en prácticas qué significaba todo aquello pues que un contrato que firmaron cientos de becarias y becarios vascos indefensos cuya misión era hacer un trabajo que debería de culminar con la lectura de sus tesis doctorales a modo

fueron asaltados de golpe sin explicaciones y retroactivamente por alguna autoridad ministerial no voy a entrar

un contrato que otro si los predoctores están en prácticas o hacen obras y servicios no voy a entrar en ello lo fundamental

y les cambiaron sus condiciones retrospectivamente con nocturnidad y eso ocasiona desorientación eso ocasiona desaliento eso ocasiona sensación de estar sometidos a los vaivenes de los deseos de otros y en definitiva

y eso se mire como se mire no está bien eso se mire como se mire a eso no hay derecho porque además no se ha dado ninguna explicación

se movieron la conferencia de rectores y los grupos parlamentarios del congreso de los diputados y lograron como consecuencia que el dos o el tres de marzo los contratos predoctorales volvieran a su formato original restaurándose de alguna manera la justicia

y el cumplimiento de la palabra dada cuando se firmaron aquellos contratos los grupos parlamentarios del congreso suscribieron una moción que se firmó por unanimidad

o no nuestro grupo parlamentario entiende que aunque todo ha vuelto al estado primigenio

pendiente por resolver una situación de inquietud de inseguridad cuyo motivo no es otro que el pecado original

la primera exigía la elaboración del estatuto del personal docente investigador y la segunda exigía

no habiéndose cumplido ninguna de las dos previsiones normativas la situación de inseguridad y de indefinición se consolida y eso de ninguna manera es el método para gestionar los recursos humanos que serán el futuro de la investigación

ahora bien ambas demandas de desarrollo legislativo ya se han hecho en el foro que corresponde que no es otro que el congreso de los diputados y se ha hecho por cierto por unanimidad lo que directamente nos concierne a todos los grupos parlamentarios que estamos aquí pero a partir de ahí

reiterar lo dicho en madrid no nos lleva a ninguna parte ni nos corresponde porque la política en madrid se hace en madrid y la de euskadi se hace en el parlamento vasco

como para que asuntos que se pueden mirar con la política de aquí los traigamos al análisis de la política de allá es cierto que hoy por hoy

de ahí que la transacción a la que hemos llegado se ciña a intentar buscar información aquí de los problemas que causan allí y es que hagan lo que hagan lejos de aquí si el cambio de formato de contrato causa objetivamente inquietud

en las que tantas esperanzas ellos y nosotros hemos depositado debemos empeñarnos en trabajar para que esa inseguridad no vuelva a producirse por todo ello proponemos que nuestro gobierno agrupe los datos de todas y todos los becarios predoctorales que pueblan los centros de investigación

o que estén en otros lugares pero que tienen becas otorgadas en euskadi para que podamos estudiarlos

y a un diagnóstico del problema a partir de ahí podremos aportar propuestas de solución con nuestros recursos que quizás puedan permitir desde aquí y para aquí

podemos debatir sobre nuevos encajes jurídicos transferencias pendientes o cualquier aspecto normativo económico o administrativo que aporte

en las últimas décadas pero que necesita todavía de muchos ajustes el gobierno de madrid tiene hoy por hoy

y por tanto el parlamento de madrid tiene responsabilidad en el asunto y en ello está

en tanto dice que todo lo normado en esa ley lo es sin perjuicio de los transferido a euskadi

lo más relevante del caso que estamos tratando que no es otro que la tipología de contratos

ya es un contratiempo serio en sí mismo nosotros no podemos quedar solo a la espera de que lo miren y lo arreglen sino que debemos trabajar para mirar con ojos de aquí

de eso va la transacción que hoy hemos firmado en definitiva esta transacción propone trabajar para hacer mejor y más justo

pero en este caso aunque resulte paradójico mejor si lo hacemos alejados del método científico porque aunque sea para ayudar a científicos que hacen ciencia resulta que y tal como dijo marcus jacobson la ciencia puede descubrir lo que es cierto pero no lo que es bueno

que es precisamente lo que nosotros tenemos que intentar muchas gracias

vamos a ver nos encontrábamos ante una primera

presentada por eh bildu una pnl que la verdad decía cosas como demostraré a continuación no eran exactamente ciertas

luego nos hemos encontrado con esta enmienda de transacción

hay una cosa que me hace hasta gracia empieza así

bueno vamos a ver todos nosotros estamos en el congreso de los diputados y allí se dieron todas las explicaciones que había que dar claro

es imposible que alguien entienda algo si no quiere escuchar pero tan se escucharon

en el congreso que luego se fue capaz de firmar una moción por unanimidad

que es un miembro del grupo socialista pregunta sobre este tema

lo primero que tenemos que decir es que los firmantes de ese contrato las universidades y el doctorando es decir no es la administración y el doctorando aquí no es el gobierno vasco y el doctorando no es y el doctorando en desarrollo de la ley del dos mil once que es la ley de ciencias sobre todo de su artículo veintiuno se puso en marcha

la seguridad social encuadró a estos trabajadores en el artículo cuatrocientos uno que es un artículo

por obra y servicio bueno

pues protestó el consejo de rectores de las universidades españolas

y afortunadamente el ministro pudo enseñar el acta en el que el consejo

españolas que en este caso son como la patronal porque son las universidades las que firman los contratos

pudo mostrar documentación que no sea un contrato de obra y servicio sino que sea un contrato de

es decir cuando se dice del inexplicable cambio se explicó hasta con documentación la patronal que es el consejo

españolas solicita solicita

no es el gobierno el que se le ocurre hacerlo pero es más como demostró

lo demostró con papeles pero como contó además a los rectores se les dejó bien claro que no son los epígrafes administrativos los que dan derechos y deberes es la ley la que da derechos y deberes es la ley y en este caso el artículo veintiuno de la ley de ciencias

entonces vamos a ver qué derechos y deberes daba la ley

mociones que se pierde el derecho a percibir una indemnización al finalizar el contrato laboral a ver en un contrato laboral de este tipo

y no conlleva una indemnización después lo que conlleva es el derecho a paro conlleva el derecho a paro y efectivamente estos trabajadores cotizaban ocho coma tres por ciento de su nómina para paro y cuando terminaban el contrato

a paro por un lado por otro lado tenían las mismas condiciones de asistencia sanitaria en el extranjero que cualquier otro

español que era la tarjeta sanitaria europea

y luego hay que prorrogarla sí que hubo alguno que todavía no había firmado el contrato y por tanto solamente se les dio un certificado como explicó

pero tenían las mismas coberturas que la otra luego el que tiene

que comunicar las modificaciones en los contratos es el que contrata en este caso las universidades que vuelvo a repetir están las actas

de que se cambiara el contrato laboral vamos a ver claro lógicamente a los doctorandos bueno otra cosa lo que no podemos olvidar también

formativo para realizar una formación y eso ya venía en la ley de dos mil once entonces lógicamente

los trabajadores no estuvieron de acuerdo con este cambio pedido por la patronal que son los rectores incluido nuestros rectores y entonces el uno de marzo

de empleo y de seguridad social se reunieron con los

para decirles que si ellos querían como eran la patronal podían volver al modelo anterior que al gobierno le daba igual porque los derechos y deberes de esos trabajadores los garantizaban la ley no el epígrafe y la ley era bien clara luego les hablaré del salario

esta vez que mostraran que había un acuerdo con los representantes de los trabajadores

efectivamente se logró ese acuerdo y al gobierno que le daba igual y que lo único que hizo fue atender a la petición de los rectores que eran la patronal y que eran quien se lo tenía que comunicar a sus empleados

al artículo cuatrocientos uno y es más tan no cambia

el epígrafe los derechos de esos trabajadores que como me queda poco tiempo

no cambio tampoco cambio las condiciones de sueldo que son las siguientes los dos primeros años esto viene en la ley

por lo menos luego cada universidad puede pagar lo que quiera pero el suelo

es el cincuenta por ciento del convenio que será poco pero la ley lo que hace es proteger ese suelo luego la upv o quien quiera puede pagar mucho más el tercer año

el sesenta por ciento del convenio y el cuarto año el setenta y cinco pero

entonces la universidad puede pagar lo que quiera lo que no puede pagar es menos que eso y luego ni en el peor de los casos por supuesto

el salario mínimo eso lo tengo por aquí pero es una cosa así entonces

que es vuelvo a repetir es la ley de dos mil once ley de ciencias innovación

el cambio de epígrafe fue la petición y lo demostró el ministro de la patronal de los que firman los contratos

por qué cree usted que fue eso pues no lo sé hay mundos muy cerrados donde se sienten agredidos cuando

a mí es lo que se me ha comunicado pero vamos es lo que se me ha comunicado y por eso fue por lo que la administración cambió del cuatrocientos uno al cuatrocientos veinte

demostrable con los documentos y luego cuando los doctorandos mostraron su insatisfacción como digo

aclárense que es lo que quieren pero por favor tráiganos el acuerdo de todo el sector y efectivamente se trajo todo el acuerdo del sector y se pasó a lo que al principio había decidido el gobierno

que fue la verdadera decisión del gobierno entonces

porque aunque aquí pone lo de la inquietud provocada por la inexplicable modificación

que todos lo hayan entendido y entonces votaremos a favor muchas gracias

hori ontzat hartzea eta aurrera egitea la acción de inhibirse del partido popular ya la conocíamos

sí que vamos a insistir en que sí que nos parecía oportuno que en esta cámara

por los grupos que también estamos en esta cámara muchas veces oímos aquí hablar de bilateralidad etcétera y entonces nos resulta incomprensible

cosas que han hecho allí y que por lo tanto vamos a ocuparnos nosotros de las cosas de aquí estas cosas hechas allí como ha dicho el señor tellería sobre todo están hechas por alguien lo importante no es dónde en nuestra opinión

y por qué las ha hecho y por lo tanto nosotros pensábamos que sí que era importante que esta cámara se dirigiese al gobierno de madrid a pedir explicaciones por estos cambios que se hicieron y como todos los grupos han defendido también aquí fueron nocivas

predoctoral y hay una serie de cuestiones que nosotros no compartimos desde luego con el partido popular

de la iniciativa es lógico y entendemos que vayan a apoyar la iniciativa todos los grupos por lo que dije al principio de mi anterior intervención

muy simple que pide muy poquita cosa y a la que nadie nos podemos oponer luego veremos con el resultado de ese estudio supongo que todos los grupos

no tienen indemnización yo hasta donde sé los contratos de obra tienen

señora bengoechea una indemnización de doce días por año los contratos

la situación de indefensión jurídica en la que se encuentran los trabajadores en general y en concreto

en el mundo científico quien tiene que modificar el contrato nos dicen también que es el que contrata lo que no nos parece de recibo es que se le modifique el contrato sin comunicárselo a la otra parte si yo tengo un contrato es un contrato entre dos partes quien me contrata

y todos hemos visto que los contratados en este caso se enteraron por la prensa o cuando fueron a ver su vida laboral por casualidad o porque la solicitaron eso desde luego no es de recibo en absoluto y por lo tanto razones suficientes para pedir explicaciones sin más eskerrik asko

y yo digo que fuimos muchas las fuerzas políticas que protestamos

aquellos que tenían representación en el consejo sino más allá de eso todos los que teníamos representación en el congreso de los diputados hablaba usted de contrato de obras y servicios en fin a mí me parece que es tener una visión excesivamente mercantilista de algo que creo que tiene indudable relevancia como es el papel de los investigadores en este

de un investigador cuando hay investigadores que dedican toda su vida a investigar sobre una sola cuestión

de contratos formativos pues en fin es cierto que habrá muchísimos jóvenes que dediquen su labor investigadora

es un conocimiento colectivo porque al fin y al cabo es un conocimiento que tiene

social una repercusión científica por tanto hay pocas profesiones que tengan un componente de tanta generosidad como la profesión de investigador sea cual sea en el ámbito en el que la realiza por tanto

no solo adquiere conocimiento el investigador aporta conocimiento crea conocimiento a esta sociedad por tanto tratarlo de manera tan

frívolo esa labor acaso no merece un reconocimiento

un reconocimiento laboral acaso esos investigadores no merecen tener un estatuto que reconozca unos derechos acordes a la labor que

la diferencia entre ustedes y nosotros sea que ustedes ven a esos investigadores a esos trabajadores

señora bengoechea sigue siendo inexplicable

dijera que se había pedido la conferencia de rectores que puede que sí lo mismo que luego lo hace

si no pone ni quita derechos para qué lo cambió para qué lo cambió

a los becados a la parte contratada qué tenían que ocultar o qué pasaba

cambiarle el formato y si le dicen que no cambia nada

y le voy a decir más está aprobado por unanimidad

con el objetivo le piden al gobierno previsiones en materia de personal de investigación para que no se vuelvan a repetir situaciones de precarización

o de inseguridad jurídica luego algo había lo votaron ustedes lo votaron ustedes y yo simplemente

en madrid todos nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir no vamos hacer un mono de repetición de lo que hacen en madrid

simplemente por eso me he empeñado en no ya lo hacemos en los discursos

quién es el responsable vamos a intentar ver qué podemos en la capacidad que tengamos de poder aportar nosotros muchas gracias

zurea da hitza bueno vamos a ver primero a la señora larrion mire sus palabras destilan tanto

tanto esto que es que ni me molesto estamos acostumbrados estamos acostumbrados entonces claro pues yo creo que lo consideramos casi como una discapacidad ustedes tengan cuidado porque el odio es una discapacidad

deseo una recuperación y que se quiten el odio al representante del grupo socialista le diré que ha hecho un encendido

dice que es la profesión más generosa bueno los bomberos también son muy generosos

que los científicos sean muy generosos pero respecto de lo último que usted ha dicho

en política la forma de perder un debate es con los juicios de intenciones triste forma de hacer un debate qué confesión de no tener argumentos entonces pues mire usted mismo siga debatiendo con juicio de intenciones

convencerá a nadie porque es el argumento de los que se quedan sin argumentos los juicios de intenciones por lo demás vuelvo a repetir

esa moción en el congreso de los diputados porque estábamos de acuerdo y aquí

y por qué se cambió el epígrafe y por qué se cambió el epígrafe por favor pregúntenselo al consejo

españolas que lo pidieron y que además como contratantes eran los obligados de comunicarlo no la administración y como usted ha dicho

lo pidió el consejo de rectores se cambió se dejó bien claro como dijo el ministro

que ese cambio de epígrafe no quitaba derechos que los derechos los daba la ley los daba la ley y es que hay que pedir explicaciones

podemos pedir que comparezca el consejo de rectores de las universidades españolas y preguntarles ustedes por qué quisieron

se pasara al cuatrocientos veinte y cuando vieron que había sido un error

volvieron corriendo a decirle al gobierno oiga ustedes lo habían hecho bien

por favor vuelvan a hacerlo reconocieron su error el consejo de rectores de las universidades españolas son ellos los que tendrán que dar explicaciones y no sé si me queda alguien ah sí me parece que los señores de podemos

bueno pues lo que le he explicado lo del consejo de rectores no mire

bien que me haya dicho eso me da usted pie para una cosa yo estoy usando el masculino genérico y creo que tengo tanto derecho a usarlo como ustedes usan el femenino genérico

porque uno de los hombres de su grupo salga y hable en femenino tiene todo el derecho del mundo a usar el femenino genérico igual que yo a usar el masculino genérico si yo le respeto su femenino genérico respéteme usted a mí su masculino genérico

la convivencia y la tolerancia muchas gracias señora presidenta eskerrik asko bengoechea andrea

señorías presento en nombre del grupo popular esta proposición no de ley que hace referencia a la grave situación generada en los viñedos del territorio histórico de álava

de los últimos días de abril digo heladas porque en torno al veintiocho de abril

hubo varios episodios de heladas que afectó a frutales legumbres y cebada principalmente también lo que más impacto fue la del día veintiocho donde se vieron afectadas las viñas de rioja alavesa especialmente los territorios de

samaniego aproximadamente en torno a ochocientos familias

de las que dos mil cien estaban aseguradas en el txakoli de ayala también tuvo su efecto la helada y se centró principalmente en amurrio y en algunos puntos de llodio y okendo

los primeros días la situación parece estabilizada el consejo regulador habla de tranquilidad prudencia y reflexión axioma a practicar para afrontar la recuperación del viñedo

comentan los productores que se dieron las condiciones para una especie de tormenta perfecta helada primaveral fuerte y muy tardía una viña adelantada por el buen tiempo de las semanas anteriores con un desarrollo más avanzado de lo normal a esa fecha con un desarrollo

salió el sol lo que deshidrató completamente las hojas con un efecto quemado según los servicios técnicos de la casa del vino de laguardia aseguran que los daños alcanzarán a un tercio de viñedos de rioja alavesa el alcance total de los daños

las viñas afectadas están teniendo un comportamiento muy positivo y a esto está contribuyendo

y las últimas lluvias trabajo de campo que va a ser muy importante en el transcurso de toda la cosecha porque el comportamiento de la viña no va a ser el mismo que en situación normal

dos mil diecisiete será un año que convivirán dos cosechas dos vendimias

qué podemos hacer desde las administraciones pues

inicialmente al ver la viña al día siguiente sufrieron un shock importante como decía el comportamiento está siendo muy positivo

necesidad de tener contratado un seguro para explotaciones y producciones agrarias y también para el viñedo en el viñedo el contrato del seguro es más elevado y por lo tanto

es lo que retrae muchas veces a los productores a contratar un seguro porque les supone una inversión importante mesedez

en estos momentos no llegamos a un cuarenta por ciento de aseguramiento en el viñedo esto es un problema según agroseguros en los partes de afección

compartimos la idea de concesión de ayudas para incentivar la contratación de seguros también

mucho tiempo en esta cámara insistiendo en la necesidad de contratar seguros es importante también estudiar

granizadas ver aquellas posibilidades de modificaciones tras efectos climatológicos adversos

consideramos interesante estudiar medidas de protección para las viñas

medidas que puedan tener un buen comportamiento en nuestro territorio y que puedan ayudar a proteger las explotaciones lo que

en el sector primario que es muy necesario porque nos ayuda a minorar pérdidas mantener calidad mantener el nivel óptimo de producción evitar enfermedades

donde nuestros centros de innovación deberían trabajar y poder acercar en este caso el sector vitivinícola

en calidad cantidad y de manera sostenible insistimos

es la enésima vez que insistimos porque esta ley se aprobó en el dos mil ocho hay unos apartados específicos de promoción de

hablamos en esa ley también en el artículo ochenta y cuatro del fondo de catástrofes y cómo regular para

que se consideren que son catástrofes también hablamos de unos fondos de compensación en el artículo ochenta y tres que tampoco están desarrollados

tantos artículos sin desarrollar sorprende sorprende no este gobierno han pasado otros gobiernos pero nueve años y que aún hoy haya artículos sin desarrollar pues la verdad que nos da qué pensar que no hay interés porque sí que creemos que es

era que eso estuviese reflejado en una ley que se desarrollase y que estuviese ahí para ocasiones

en definitiva señorías el interés del grupo popular con las iniciativas que presentamos ante esta helada que hemos presentado en juntas generales de álava para aquellas medidas que se pueden poner en marcha desde las diputaciones como son medidas

los pagos hacerlos fraccionados y otras medidas que se pueden aplicar como

la diputación junto con el gobierno vasco de créditos lo que se llaman los créditos blandos

presentar unas medidas que corresponden a esta

diputaciones pueden enfocar medidas de apoyo al sector

el interés en contribuir y mantener la estabilidad económica de los productores y de la producción del sector vitivinícola afectado tanto en rioja alavesa como en ayala

a la iniciativa hemos llegado a una enmienda de transacción que yo creo que recoge

nuestro interés ha sido recoger el informe que ustedes proponían porque

puede caber perfectamente y la enmienda de transacción a la que hemos llegado dice lo siguiente primero que en cumplimiento de la ley de política agraria y alimentaria de dos mil ocho se elabore en el plazo de cinco meses el reglamento que desarrolle el fondo de catástrofes y su sistema de gestión en su punto dos décimos que en coordinación con las diputaciones forales acuerdo de la comisión de política agraria ponga en marcha campañas de sensibilización sobre la importancia de contratar seguros para las explotaciones y producciones agrarias

así como de asesoramiento técnico formativo para prevenir y en su caso paliar las consecuencias de los daños en rendimientos que pudiera sufrir el sector productor y se elabore un informe que contenga todas las medidas desarrolladas en esta área y se envíe al parlamento es verdad

en campañas de sensibilización pero no avanzamos en los porcentajes de aseguramiento de las producciones

que depende exclusivamente de esta producción que es más grave todavía porque si realmente hubiese

en esta producción las consecuencias serían importantísimas recordar que la producción del vino y todo lo que está

empleos y que son una población muy importante la que se vería afectada con muchos sectores

y por lo tanto creo que merece la pena que se haga un esfuerzo porque estas producciones y explotaciones

que hagan que se mantenga la estabilidad de la producción y de los productores por lo tanto creo que estamos hablando de algo muy serio que lo repetimos como si fuese una cantinela

de asegurar la producción y las explotaciones también décimos en el punto tres de la enmienda de transacción incentivar la contratación de seguros en los diferentes subsectores agrarios a través de diferentes medidas de concesión de ayudas

por las heladas en esta campaña proponiendo modificación de las normas de campaña dos mil diecisiete y se estudie la posible flexibilización excepcional del rendimiento de viñedos

porque es verdad que la dimensión de las bodegas son muy diferentes hay bodegas de unas dimensiones enormes y bodegas muy pequeñas y estas medidas

por lo tanto esa posible flexibilización

exactamente qué impacto pueden tener en un tipo de bodegas en otros

de si esas medidas son favorables o no para el sector vitivinícola

de los grupos que han presentado enmienda para formar esta iniciativa de transacción y

adverso climatológicamente hablando nos encontramos con una moción pidiendo al gobierno las medidas que tiene que tomar para

para tomar medidas vayamos a tomar medida dentro de un protocolo a tiempo y consensuadas como no puede ser de otra manera con los diferentes agentes

prioritaria del gobierno no haría falta en principio tener que hacer mociones cada vez que

la historia se repite una vez más otra vez más y los datos además están encima de la mesa datos que demuestran la indefensión con la que afronta el día a día el sector primario una indefensión que no es exclusivamente climatológica como no es también por falta de seguridad es una incertidumbre por

en todo unos datos muy concretos en las últimas seis campañas cuatro campañas han tenido un efecto meteorológico adverso solo se han librado dos y justo justo eso nos está diciendo

eso nos está diciendo que tenemos encima ya el más que famoso cambio climático que nos cuesta hablar de él pero está encima de la mesa y hoy he desayunado con él y en un periódico también hablan del cambio climático

cómo este cambio nos va a afectar de hecho cómo a las viñas son las primeras producciones y en la manera más directa que está afectando ya un cambio climático que aun no siendo el debate central de hoy efectivamente

un cambio climático que se da por muchas más cosas pero por una de ellas es la negligencia de los grandes gobiernos y donde los intereses económicos

una responsabilidad que en cierta medida sí que nos cae o nos corresponde a todos y a todas hacerle frente así que algo está claro que el sector primario sufre de manera directa las consecuencias de estos episodios está claro sequía granizo heladas

por lo tanto y como planteamos en nuestra enmienda una enmienda yo creo que conciliadora y con intención de aportar

hay que tener datos para poder hablar y tomar decisiones en la medida que podamos lo más frío posible no tomar decisiones en caliente

y porque hasta la hora de vendimiar no lo sabremos entonces yo desde aquí sí que pediría menos

y vamos a basarnos sobre todo en los datos que tengamos encima de la mesa una vez más nos encontramos con un duro golpe inesperado pero no inesperado es inesperado por lo tarde en que se produce pero no por lo habitual

por lo tanto nos toca prever prever porque van a venir y

en cuanto al tema desde luego estamos de acuerdo en el fondo cómo no podemos estar de acuerdo pero no estamos tan de acuerdo en las formas desde eh bildu en nuestra enmienda

proponíamos una comisión donde todos los agentes que rodean nos solamente al vino sino también al txakoli incluso diría que al sector primario en general porque también la sequia está afectando también en la llanada bueno una comisión para peritar de forma certera para que los datos estén encima de la mesa qué ha sido cuántos daño ha habido

estos daños otro estudio para prevenir si estamos hablando de las causas también tenemos que hablar de las consecuencias vamos a hablar de medidas preventivas que en principio se deben valorar pero sobre todo diríamos que hay que buscar medidas a la carta se deben individualizar todas las acciones para prevenir estos episodios

qué hacer no nos podemos olvidar con los técnicos en el sector que saben también para dónde que son los que mejor van a asesorar y de hecho lo están haciendo ya hacía buscar la viabilidad de la producción

hablábamos de seguros yo veo un cierto cambio en las proposiciones iniciales hasta las de hoy y en el tema de los seguros lo he visto desde el minuto uno es muy complicado juzgar hay por un lado están las personas que han perdido toda la cosecha y no habían asegurado vale

por otro hay personas que tenían las viñas asegurados pero

vendrá después el año que viene cuando no tengan vino para vender o cuanto tengan menos

está claro que todas las hectáreas no están aseguradas ya vamos los datos el ochenta por ciento hablamos en la llanada de cultivos pero en rioja alavesa bastante menos pero no es porque no haya conciencia

lo que no tenemos es dinero o sea lo que no es rentable si fuese rentable y se vería como una inversión en vez de cómo un gasto las viñas estarían aseguradas y no estaríamos hoy debatiendo aquí cómo asegurarlas si hacer campañas de concienciación o no sencillamente porque las campañas de concienciación no funcionan

si no sabemos que vamos a poder afrontar ese gasto durante el año el dinero que el gobierno debería o debe instar

todas las hectáreas sin dejarnos una deben estar deben tener garantizada la subvención para poder asegurar y eso sí que sería de verdad una medida efectiva

tenemos un asesoramiento técnico importante aprovéchenoslo y pongamos encima de la mesa planes de viabilidad a la carta

porque si algo el sector primario está lo decía hace un momento es que está concienciado

sus cosechas por lo tanto con un asesoramiento eficaz y con unos precios justos casi casi sería suficiente

bultzatzeko estos episodios si algo tienen de malo es que a los pobres y a los pequeños y a las explotaciones familiares les empobrece mientras algunos siempre se van a enriquecer y casualidad o no los pequeños agricultores y agricultoras de araba están en desventaja frente a las grandes bodegas

para poder entrar el mercado y frotándose las manos viendo la próxima vendimia

y el trabajo en la tierra pues no nos queda otra que empujar que proteger que asesorar bueno yo creo que en eso podemos estar de acuerdo hablábamos en el fondo estamos absolutamente de acuerdo

siempre entonces bueno ya por acabar la valoración de la proposición y las enmiendas las voy a hacer en la réplica pero sí que me gustaría que nos explicará un poquillo más el punto cuatro

que ese punto cuatro nos lo expliquen porque no entiendo muy bien eskerrik asko eskerrik asko lópez de arroyabe andrea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

presidenta señorías la iniciativa que nos trae la señora

a lo que todos conocemos en relación con las heladas

han sufrido las viñas y también es oportuna en el tiempo porque

un elemento mucho más concreto de valoración de lo que ha pasado en relación a lo que pudo ser aquella alarma

y por lo tanto estamos en condiciones de hacer un debate mucho más

las soluciones es también adecuado que este parlamento

cartas en el asunto como lo han hecho otras instituciones hay una institución muy concernida al respecto que es la diputación foral de álava las juntas generales

hablar de las heladas y de la repercusión que tiene en los productores en los bodegueros en la parte agraria pero también en la parte industrial del vino

pues es algo que afecta y que compete de una manera importante a este parlamento por lo tanto esta es una iniciativa que a nuestro modo de ver tiene

he mencionado porque hay que actuar de una forma conjunta de una forma coordinada para que

paliativos sean los más efectivos posibles para la ciudadanía que se dedica en rioja alavesa a este menester de la producción de la uva

en vino la propuesta que traía la señora ocariz de alguna forma está recogida en la enmienda transaccional hay algunas variaciones

porque es cierto que tenemos una ley de política agraria y alimentaria desde el año dos mil ocho que no está reglamentada

que también ha presentado la señora ocariz que pide que se reglamente el conjunto de la ley pero bueno es cierto que el reglamento de catástrofes está sin hacer y hay que hacerlo y aunque en estos momentos no estemos hablando de una situación catastrófica sí que aprovechando las circunstancias

parece adecuado el que esto se desarrolle y por eso se ha planteado en una acción de consenso entre tres grupos políticos que debiera de agradar al conjunto de la cámara en un plazo determinado se proceda al desarrollo de esos reglamentos se plantea también incitar

influir para que el conjunto de los productores hagan seguros es cierto que los seguros tienen determinados problemas

la solvencia económica de un productor para poder hacer sus seguros sino que luego también los seguros limitan las hectáreas que se pueden asegurar limitan el precio que se puede obtener por kilo de uva bueno tienen

que la acción de la política o la ayuda de la política debiera de también tratar de ayudar a resolver los seguros debieran de tener una capacidad de asegurar mucho más real a lo que cuesta producir uva

en situaciones como estas porque quienes están en la peor de las situaciones quienes han perdido todo no solamente han perdido su forma

su sueldo sino que se van a ver sometidos a tratamientos especiales específicos a trabajos especiales específicos para poder enfrentarse con los elementos que dañan que no es solamente el que no salga la uva sino que son muchas más cosas que la propia producción

la parte de relación a la invitación a que se hagan

al máximo y a poder ser a la totalidad de las viñas los seguros tiene que tener también esa vertiente de acompañar a mover a algunas resistencias que desde

todo ello esté en una razón más lógica con los costes y con las producciones con el desarrollo de la producción que tiene cada uno de los productores es evidente que

para ayudar a los seguros si se quiere multiplicar prácticamente el número de seguros que hay en estos momentos

más recursos económicos hará falta de más partidas presupuestarias

sobre el que hay que pensar y hay que intervenir sabiendo que los presupuestos de las instituciones ya están hechos pero que se necesita un reforzamiento económico para poder ayudar a que se hagan más seguros no reduciendo las subvenciones que se hacían manteniéndolas y por lo tanto dotándolas de más recursos económicos y después se plantea una cosa que efectivamente ya bildu ha pedido que se le explique y que no sé hasta dónde

darse la explicación entre otras cosas porque es un asunto complejo pero yo creo que es razonable que se aborde y es que haya una cierta flexibilización de los rendimientos de los viñedos que está referido fundamentalmente a las características a las limitaciones

establece para las explotaciones de esos viñedos para las cepas por hectárea para los kilos por hectárea

bueno es efectivamente un asunto complejo en todo caso además esa parte

pero yo creo que es bueno que se invite

más allá de hasta dónde se pueda llegar porque es cierto que lo que puede generar ayuda en un caso puede generar agravio comparativo

se lo puedes flexibilizar al que está perjudicado pero también al que no lo está y obviamente esto no es fácil regular

del consejo regulador y por lo tanto que sea allí en el consejo regulador de rioja donde se resuelva en definitiva estamos ante un problema muy importante la rioja alavesa en volumen económico en capacidad industrial

producto interior bruto aporta una

y una calidad considerable a lo que es nuestra economía y es razonable que el parlamento vasco se haga eco de ello y trate en la medida de sus capacidades y en coordinación con otras instituciones y también a otros organismos fuera de la política como los seguros o como el consejo regulador a que entre todos veamos cómo tratar que el año

no sea una repetición del dos mil diecisiete si el tiempo vuelve a producir este tipo de situaciones y por lo tanto como es mejor

de alguna manera hoy estamos lamentando lo que ha sucedido pero estamos también en la obligación y creo que en el acierto de tratar de prevenir lo que pueda pasar para que no se generen estas tensiones económicas
y sociales muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

bajo cero en ciertas zonas de rioja alavesa y el valle de ayala ocasionando gravísimos daños en las viñas en pocas horas los viticultores de baños de ebro

y labastida veían cómo perdían sus cosechas en ayala municipios como amurrio llodio y okondo también perdían la ilusión al comprobar las pérdidas que tendrían

e intensa y las consecuencias en la cepa fueron letales porque cortó su vegetación los daños fueron mayores porque la brotación se encontraba muy adelantada para la época de manera que los pámpanos y los pequeños racimos que comenzaban a brotar se quemaron ahora la planta debe recurrir a las reservas del tronco de las raíces y del suelo

pero sin humedad esto se complica todo acarrea una espergura mucho más complicada y que el trabajo se triplique trabajo que a su vez se traduce en más costes algunos viticultores conscientes de sus pérdidas incluso se conforman con que el año que viene haya poda el mismo día de san prudencio

para comprobar de primera mano los daños que la helada había provocado y a hablar con los viticultores y alcaldes de los municipios afectados y al día siguiente hizo lo propio en amurrio durante los días posteriores gobierno vasco y diputación se reunieron con agentes sectoriales para valorar la situación y las posibles consecuencias de manera que desde el primer momento se está trabajando de forma coordinada y en contacto con los afectados

acabó con gran parte de la producción y el ánimo de los viticultores de ayala y rioja alavesa pero también debemos recordar que otros sectores como el cereal la cebada

todavía está por determinar el impacto rioja alavesa vive por y para el vino

fue generalizada debido a la orografía de la comarca el nivel de afección

inicialmente se habló de daños en torno al noventa por ciento de la producción y tal vez sea así en ciertas zonas en otras quizás del cinco por ciento o de cero en cualquier caso debemos confiar en la recuperación ya que hasta la vendimia como se ha comentado no sabremos exactamente el impacto real la cepa es una planta fuerte resistente con profundas raíces con una capacidad de adaptación excepcional y duradera además que

y que por suerte se recupera gracias obviamente al cuidado esfuerzo y mimo de los viticultores que se esfuerzan en mitigar el daño y

como es lógico esta situación ha provocado incertidumbre tristeza y desánimo en la comarca esperar sin desesperar y sin dejar de trabajar es lo que tienen por delante los agricultores están por otra parte también tan acostumbrados y desprotegidos ante las inclemencias meteorológicas

la visión ha cambiado y aunque las viñas siguen estando débiles por la falta de lluvia han evolucionado algo y por ello insisto en que hasta la campaña no sabremos cuál será

la cantidad de producción de uva se verá mermada pero no lo hará en la calidad sabemos que la mejor manera de proteger las explotaciones es mediante los seguros no son una fórmula secreta porque no garantizan ni devuelven la cosecha pero al menos evitan perderlo todo y permiten recuperar algo de dinero

primero por motivos culturales cuando uno sufre un desastre climatológico nunca piensa que puede ocurrirle durante cinco años seguidos segundo porque no es barato tercero porque actualmente se cobra solo sesenta céntimos por kilo

no suele hacerlo en toda la explotación y los seguros obligan a asegurar toda la explotación

asegurable y hay viticultores que aseguran sus explotaciones para ciertos efectos meteorológicos pero no frente a todos a pesar de ese cuarenta por ciento está incrementando decía la señora lópez de ocariz que no yo le digo que sí porque desde dos mil quince eran de veintisiete por ciento y ahora nos situamos en el cuarenta y esto sucede por dos motivos porque en rioja alavesa en las últimas seis campañas ha habido graves episodios en la que la producción se ha visto

como les comentaba antes nadie creía que estas circunstancias pudieran repetirse cinco años seguidos

a esta mala suerte climatológica fíjense en dos mil doce granizo dos mil trece hielo dos mil catorce piedra dos mil quince piedra dos mil dieciséis paradójicamente fue tan bueno que debido a la cantidad de uva nos obligaron a cortarla y dejarla en el campo y ahora en dos mil diecisiete

es o no es para estar escarmentados y luego el segundo motivo es gracias a la labor que está haciendo la actual diputación foral de álava que ha apostado por las ayudas para animar a la contratación cuando el pnv volvió a la diputación incrementó esas ayudas de los cuarenta mil euros que había en dos mil quince a cien mil

además ya ha manifestado su compromiso de aumentar la partida para el próximo ejercicio y mejorar las condiciones de los seguros para que sean asequibles y se adapten a una viticultura de calidad como la que tenemos

el compromiso que el partido nacionalista vasco mantiene con los agricultores y con la protección de la agricultura por todo ello hemos firmado una enmienda transaccional con el partido popular que como ya han explicado aquí bueno la comentaré brevemente para no insistir en ella pero se al gobierno vasco a que elabore en un plazo de cinco meses el reglamento que desarrolla el fondo de catástrofes sí hay interés señora lópez de ocariz y me consta que ya se tiene un borrador del decreto independientemente de eso aunque dicho fondo estuviese desarrollado a día de hoy sabemos

porque la ley de política agraria y alimentaria del país vasco dice que los beneficiarios eran quienes no estén incluidos en los planes de seguros agrarios y además estamos hablando de daños climatológicos no de catastróficos en el segundo punto

nuestro grupo considera importante que se sigan realizando para que ese porcentaje que les he comentado antes siga aumentando y nuestros agricultores estén protegidos

esta medida ya ha se ha puesto en marcha tanto en el valle de ayala como en rioja alavesa donde se han ofrecido charlas

técnicos del sector en el tercer punto también considerábamos imprescindible incentivar la contratación de seguros a través de diferentes medidas en la concesión de esas ayudas para que sea más asequible a los agricultores y en el último punto

y que se estudie esa posible flexibilización excepcional del rendimiento del viñedo que como ha explicado el señor prieto es competencia del consejo regulador que establece un cupo

los agricultores independientemente de los kilos que pueda darle la explotación

egun on guztioi buenos días a todas y muchas gracias señora presidenta

se produjeron fuertes heladas que afectaron a una importante zona de rioja alavesa así como en el valle de ayala a los viñedos de txakoli y aunque no sea objeto de esta iniciativa

hay que recordar que afectó también a cultivos extensivos de guisantes habas y cebadas tempranas en la llanada y valles alaveses esta situación

pone en riesgo la renta de todo el año de más de ochocientos familias que dependen de los resultados de un cultivo que está sujeto al tiempo variable

heladas o granizos para empezar decir que los daños no solamente tienen que ver

sino con la situación adelantada del cultivo con una primavera típicamente cálida y una prolongada sequía que son consecuencia directa del cambio climático nos gusta hablar como ya se ha señalado en las anteriores intervenciones se ha visto afectado el noventa y cinco por ciento del viñedo y todavía no sabemos qué tanto por ciento de las plantas se podrán recuperar a pesar de que se produzca una merma de la producción de entre un treinta y cinco y un cuarenta y cinco por ciento para esa recuperación hay que tener en cuenta las reservas

las raíces y el suelo para formar nuevos brotes verdes y la realidad es que apenas había agua en el suelo y la cosecha del dos mil dieciséis

normales hicieron que la viña llegara a abrir especialmente debilitada ahora toca atender

y manualmente porque tienen diferentes grados de afección contar con conocimientos y técnicos

todas las instituciones que junto al sector ayuden a hacer la labor más adecuada posible para el viñedo

y mirar al cielo para que llueva quedan meses por delante de espera para saber cuánto se va a recuperar

la pregunta que nos hacemos es qué podemos hacer desde las instituciones y desde esta cámara

que se han producido en el sector desde elkarrekin podemos creemos que es fundamental incrementar las campañas de sensibilización entre el sector viticultor sobre la importancia de tener contratado un seguro de viñedo sabemos que está subvencionado y que a pesar de todo

la superficie asegurada siendo además en su mayoría las grandes bodegas quienes aseguran y no el pequeño viticultor

la contratación de estos seguros ante la incertidumbre que generan los fenómenos meteorológicos

y la gran variabilidad de episodios climáticos que se dan en primavera el seguro es el mecanismo de cobertura idóneo

a estas situaciones que conocen y sufren no pueden jugarse la renta de un año a una carta teniendo la opción de asegurar desde lo que nos compete hay que contribuir a incrementar las campañas a favor de asegurar el viñedo es importante también seguir incrementando el apoyo económico para la contratación de los seguros de viñedo

para conseguir mejorar en la garantía de aseguramiento agrario y en las tarifas es cierto que el seguro agrario agroseguro no es una competencia transferida al país vasco

alimentación y medio ambiente que ideó una estrategia para toda la viticultura española

además de tener un coste importante tampoco está subvencionado por los fondos europeos por lo que tendremos que repensar el modelo de seguro de franquicia porque tienen que asegurar toda la explotación y esto supone una inversión importante a la que no es fácil acceder en rioja alavesa hay parcelas muy pequeñas

por lo que debemos incidir en mejorar las condiciones de esos seguros que al menos pueden dar oxígeno

nos parece imprescindible trabajar en coordinación con el sector en métodos efectivos antiheladas

a la hora de trazar estrategias para combatir estos incidentes

aprendieron que el hielo se combate con viento con humo y con agua invirtieron en una balsa de agua y la instalación de un sistema de aspersores que se activan y riegan el viñedo cuando hay heladas de veintidós hectáreas tienen dieciséis hectáreas protegidas con este método

hay que trabajarlas también para rioja alavesa y no dejar el futuro en manos de la suerte climatológica también nos parece importante habilitar compensaciones fiscales

a las personas afectadas por estas heladas desde elkarrekin podemos siempre defendemos la coordinación interinstitucional y en este caso nos parece lógico

y con la participación de todos los agentes del sector se impulse la creación de una comisión técnica que evalúe los daños y coordine las medidas a adoptar y en esta misma línea también

sobre posibles medidas de prevención contra estas variaciones atmosféricas que son consecuencia directa repito del cambio climático bueno tanto la propuesta inicial

tenían bastantes puntos en común y realizaban peticiones

y viendo los antecedentes de la semana pasada en la diputación foral de álava entendí que íbamos a llegar a un consenso

sin embargo en esta cámara que nos gusta mucho hablar de la relación y de las diferentes políticas que hacen algunos partidos entre madrid y euskadi aquí me veo con la sorpresa

se llegó a un consenso y ahora estamos aquí con una enmienda transada

y con dos grupos sin transar porque uno de los puntos el número cuatro fue quitado fue rechazado

sin embargo aquí ha sido incluido y yo también necesito que me lo expliquen porque al margen de que no tiene mucho sentido cuando uno lo lee

entre ese párrafo y el inicial que presentó el partido popular tiene que ver básicamente con quitar de ahí

denominación de origen calificada rioja y ustedes señora lópez de ocariz y señor prieto saben que es el pleno del consejo regulador

de las vendimias que fijan los rendimientos de producción para las diferentes variedades y los acuerdos tienen que ser con el setenta y cinco por ciento de los votos

no van a llegar a esa mayoría necesaria saben que ese objetivo del consejo regulador de empezar con el control de rendimientos por parcelas se va a posponer al menos por un año

son ya muchas campañas en las que en las áreas con mayor mecanización menores costos menores riesgos climatológicos y mayor rendimiento

lo cual no sería cuestionable si donde se apuesta por la calidad se ganara también pero esto no será un hecho mientras no se diferencien desde la viña a la etiqueta los diversos modelos y vinos de la rioja el cambio climático ha llegado para quedarse por lo que es obvio que no se puede seguir

y es el único tratamiento preventivo que pueden hacer para los proyectos personales

entre todos nos toca pensar las estrategias y las formas que inmunicen el agro alavés frente a otro tipo de catástrofes naturales

heladas o granizos esperemos que la climatología y sobre todo el buen trabajo de nuestros viticultores recuperen el mayor porcentaje posible

en otras heladas como la de mil novecientos noventa y nueve ya citada hace unos días podíamos leer que en las viñas de txakoli hay que esperar a julio cómo evoluciona el viñedo pero que habría un veintiocho por ciento afectado y en rioja alavesa esperaremos también al análisis concienzudo finca por finca así como a que el trabajo y el clima

la materia prima tan necesaria para viticultores y vinicultores desde elkarrekin podemos queremos tender la mano y seguir trabajando no solo de forma ocasional

por las pequeñas agricultoras y productoras para que entre todas encontremos las mejores soluciones y lleguemos a un consenso muchas gracias

han hecho posible esta enmienda de transacción nos hablaba

portavoz del grupo eh bildu que bueno que esta es la consecuencia del cambio climático a mí me gusta más hablar de calentamiento global porque al final estamos hablando de un aumento de temperatura del sistema climático de los efectos

calentamiento global pero usted que conoce bien el campo sabe que eventos atmosféricos que nos han afectado a las producciones

y también ha habido ciclos que ahora tenemos un calentamiento

sean menos previsibles o sean más agresivos pero la actividad agraria ha ido ligada a eventos climatológicos adversos y ahí estamos y al hilo de esto usted me hablaba de daño catastrófico y daño no era usted

daño climatológico al final un daño catastrófico es un daño climatológico de dimensiones extraordinarias

eso sí que también hay que valorar al desarrollar la ley y el artículo porque final los daños catastróficos en muchas ocasiones es

de extraordinarias proporciones por lo tanto no va desligado de la climatología en algunos casos

es la realidad nos hablaban

del punto cuatro de la enmienda de transacción y nosotros lo que décimos en el punto cuatro de la enmienda de transacción es que

en todos los ámbitos sectoriales y administrativos también en el consejo regulador porque tiene voz y voto el consejo regulador se elige por el sector productor por unas elecciones

en el consejo participan todos en la proporción que un día determinaron

al final yo entiendo que es un sector

entiendo perfectamente que es un sector de dimensiones muy desproporcionado por eso las pequeñas bodegas están agrupadas en una organización y esas pequeñas bodegas tienen su representación

es complicada la gestión pero habrá que trabajar en post de mejorar eso y yo creo que hay abierto un camino

cómo hacemos unas calificaciones por zonas y vamos avanzando y yo le puede decir que estamos mucho mejor que hace un año avanzando en la negociación de todo ese sector

pero se está trabajando y se está avanzando por lo tanto yo soy optimista

se va a conseguir que haya una cierta normalidad y haya una cierta garantía de que los productores y bodegas más pequeñas también tengan su representación y tengan su capacidad de especificar

en sus producciones por lo tanto yo soy positiva en ese sentido y creo que estamos en un momento de una sintonía extraordinaria que no ha habido hasta ahora por lo tanto vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a avanzar

el consejo de denominación de origen establece unas normas de campaña de acuerdo con todos los productores supongo que

cada uno parte de sus peticiones y se estudia posibilidad de flexibilizar

y muy a destiempo la helada como se ha dicho aquí en otras ocasiones se ha tenido que hacer vendimia en verde forzada porque la producción venía muy dimensionada para lo que marca el consejo al final lo que estamos haciendo es en este momento que hemos tenido va a haber en algunas viñas una producción baja porque

efectivamente cómo flexibilizamos para que también pueda entrar ahí o vino que tienen del año pasado o no o sí en fin yo creo que es un sistema de gestión interna que ellos mismos son los que saben

por eso décimos que se estudie dentro del consejo aquello que desde luego no sea que favorezca al que no ha sido afectado y que el que está perjudicado

amparado o mejorado en su porcentaje creo que

realmente les debe interesar o no hay quien lo pide hay quien no en definitiva por eso décimos la posible flexibilización y que se estudie
lo dejamos ahí y sean ellos en su entorno quien lo desarrolle nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea

eskerrik asko tejeria andrea le voy a ser sincera señora lópez de ocariz cuando escribí ayer por la tarde la réplica ponía en el inicio le agradezco al partido popular que nos dé la oportunidad de transar pero cuando he llegado hoy a la mañana y me encuentro la transacción ya firmada cuando eh bildu y a elkarrekin podemos nos han dejado fuera

porque de repente que ustedes tengan algún mandato no sé de dónde para no firmar con nosotros algo que en principio los objetivos son tan claros como

incentivar medidas tal apoyar para asegurar me sorprende l soy absolutamente sincera y estoy decepcionada también no solamente

por qué porque la semana pasada vivimos una moción parecida

y era muy gracioso porque había mensajes absolutamente contradictorias o sea mientras que el pnv la semana pasada quitó la flexibilización de los rendimientos de la moción hoy la coloca

darme escalofríos en la capacidad que en una cámara o en la otra digamos cosas diferentes

los objetivos que son los mismos yo entiendo que sí lo he dicho antes señor prieto no es que no entienda el punto cuatro lo entiendo perfectamente pero dos cosas al punto cuatro primero no está bien redactado porque falta nombrar al consejo regulador

a abrir los rendimientos no se sabe tampoco a quién vamos a ver dejémosles trabajar al gobierno vasco todos sabemos que tanto por cien tiene el gobierno vasco y qué peso tiene el consejo regulador que es más bien poco las cosas aquí sean dichas el peso en el consejo regulador está encima de las grandes empresas de las grandes bodegas y si quieren les damos nombres datos y quién va a ser nuestro próximo

alavés por cierto que no garantiza tampoco nada nuestro objetivo y como eh bildu objetivo número uno es llegar a acuerdos porque vamos a poner al sector primario no solamente cuando hay una helada el veintiocho de abril por la noche sino todos los días y no es una obsesión es poner al sector primario

pero desde luego firmando unos sí y otros no y con estrategias varias electoralistas de demagogia y de hablar para quien nos quiera oír y que nos va a votar sinceramente yo no entiendo nada

con el tema del cambio climático se puede llamar calentamiento global yo creo que estos días en parís se está hablando de cambio climático es más tenemos datos encima de la mesa

pero dice que las uvas ya están siendo afectadas por el cambio climático o sea no nos estamos inventando está afectando cierto y os decía antes

por favor no dejemos en manos de cualquiera luchar contra el cambio climático es la responsabilidad de todos y todas y en ese sentido nosotros vamos a estar ahí y ya voy acabando

voy a pedir una votación por puntos si es posible los tres primeros por un lado y el cuarto por otro y

gracias presidenta solamente para añadir una idea que antes no la he expresado

durante un tiempo los productores de uva que han sido muy afectados van a necesitar también financiaciones blandas para poder mantener sus explotaciones

en la propuesta se debería de pensar sobre él y tratar de

eskerrik asko señora lopez de arroyabe no se decepcione usted porque sabemos aquí que las juntas generales es una institución

deberá saberlo igual que las decisiones cuando instamos aunque se pidan las mismas instamos a diferentes y entonces el gobierno vasco

en el consejo regulador denominación de origen rioja y por eso velará por los intereses la diputación no puede hacerlo por eso

que no aseguren los agricultores obviamente no es un capricho

que hay más de un motivo para no hacerlo aunque se vaya avanzando en ello a la señora garcía también decirle que efectivamente a quinientos metros su grupo sí que presentó una enmienda por tanto pudo llegar a un acuerdo

aquí en esta institución no tengan tanto interés como tienen allá en los agricultores alaveses no lo sé eso usted sabrá pero bueno podría haber presentado mejoras o las medidas que ustedes hubiesen

nada solo reiterar la petición del grupo eh bildu
de poder votar el uno dos y tres conjunto y el cuatro por separado gracias eskerrik asko

puntuka eskatu da ez dakit arazorik badagoen hay algún problema en votar en puntos por puntos no bale ba orduan